proportzioz kanpo diagnostikoak esaten du que ha crecido el porcentaje de la población que señala un tanto grado de dificultad para conciliar trabajo con el cuidado y el de las personas que tienen dificultades para adaptar su jornada o calendario laboral a las necesidades de cuidado o de quienes creen

el diagnóstico señala que ha crecido el porcentaje de población que señala un alto grado de dificultad para conciliar trabajo con el cuidado y el de las personas que tienen dificultades para adaptar su jornada o calendario laboral a las necesidades de cuidado o de quienes creen que la maternidad obstaculiza mucho o bastante la trayectoria laboral femenina

diagnostikoak y es que ayer nos lo decía amaia pérez orozco en una

tenemos unas edades muy tardías de emancipación las mayores de europa doblamos las tasas de desempleo juvenil con respecto a las de europa precariedad inestabilidad

mujeres que siguen condenadas a los cuidados como bien nos decía ella a los cuidados de las personas mayores de los menores

para resolver la vida y así estamos eta baldintza horietan

y poder desarrollar esos deseos del que los tenga de tener hijos e hijas

horrek suposatzen duen guzti guztiarekin y es verdad que en eso las prestaciones para la conciliación de la vida laboral y familiar y las orientadas a la corresponsabilidad en la crianza

dada la centralidad que las prestaciones económicas orientadas a este fin tienen en una estrategia orientada a la inversión en familias y en la infancia como la que ha promovido este gobierno conviene analizar con cierto detalle el impacto y el funcionamiento de las mismas porque como dice el propio diagnóstico este tipo de políticas tienen tanto en su concepción general como en su aplicación concreta

que beneficia fundamentalmente a las familias con mayor renta

el último informe del ararteko señala las dificultades en este sentido y si vamos a la ejecución

a este fin del dos mil dieciocho pues veremos que estamos muy lejos

las explicaciones simplistas que nos dio la consejera artolazabal de que como no hay niños no se piden estas ayudas no son de recibo baina gainera

la politóloga eva silván en tiempos de diagnósticos claros pues es el momento de establecer prioridades

hacer cosas y nosotras desde luego como ya hemos demostrado estamos dispuestas a tomar la iniciativa y a hacer cosas y hacerlas conjuntamente con este gobierno porque estamos hablando de un tema que es estratégico para este país estamos dispuestas a trabajar

para tener hijos e hijas que pasan por hablar entre otras cosas de empleo de calidad del acceso a la vivienda pero también de nuestro sistema de apoyo a las familias de corresponsabilidad y de conciliación y lo hemos hecho

y no tenemos ninguna duda que es para quedarse hay muchísimo camino todavía por ensanchar y avanzar es cierto pero no hay vuelta atrás por más que algunos grupos parlamentarios y sobre todo el gobierno pongan piedras en el camino o no quieran abordarlo como corresponde no cabe ninguna duda que es gracias fundamentalmente al trabajo

política la atención a las personas dependientes a niños niñas personas enfermas personas mayores o con diversidad funcional son una preocupación

las mujeres a las que históricamente se ha sobrecargado con esa

un trabajo cuyo objetivo directo es la satisfacción de necesidades y se caracteriza por la realización de múltiples tareas al mismo tiempo por una componente de gestión constante de tiempos y espacios y por la polivalencia de los conocimientos necesarios los cuidados cumplen un papel estratégico ya que todas las personas lo necesitamos en algún momento de nuestra vida para poder existir aunque esto

ciclo vital según nuestra escasa o avanzada edad o según nuestro estado de salud

es irreal ya que todas y todos somos interdependientes no voy a entrar en datos ya que ya lo ha hecho la señora

me gustaría decirles que los cuidados forman parte de ese andamiaje del sistema económico que tenemos es imprescindible cualquier modelo económico social sin incorporar el trabajo infinito de cuidados y elkarrekin podemos así lo ha puesto sobre la mesa con iniciativas en comisiones o en este o colocando por primera vez el derecho a los cuidados y el derecho de las mujeres a no estar obligadas a cuidar en una ponencia de autogobierno en la que nadie se había planteado hasta entonces que este tema fuera digno de un estatuto no hay proyecto de país si no se incluyen los cuidados pues todo esto que parece tan evidente y tan de sentido común

objetivas todavía se encuentran con resistencias y con obstáculos para hacer políticas que den respuesta a esta realidad

quienes defienden una organización económica y social que brinda buenos beneficios y poder a unos pocos y obliga a todos los andonis de euskadi a no ver a sus familias

algunas resistencias son frontales como cuando el gobierno promueve ayudas para que las mujeres dejen sus puestos de trabajo y se dediquen a cuidar por cierto

este problema señora artolazabal pero es cierto también que los obstáculos cada vez son más tímidos y elaborados porque la demanda y reivindicaciones de la sociedad en la calle es contundente

para adaptarse a los tiempos y los oleajes feministas la incapacidad o la nula

pero obstaculizadora que pone piedras en el camino para afrontar este tremendo desafío que tenemos entre manos las responsables políticas del dos mil diecinueve la iniciativa que debatimos hoy se presentó a principios de febrero y pone en valor y reclama al gobierno vasco de uno de los acuerdos que se alcanzaron hace más de un año en el pleno monográfico sobre política familiar y desafío demográfico está muy bien eso de votar en el parlamento que sí

entre medias elkarrekin podemos presentó una interpelación sobre los cuidados y el siete de marzo conseguimos un acuerdo unánime a partir de una moción que yo

es pertinente recordar esta moción porque está estrechamente relacionada con la proposición

en primer lugar porque insta a todas las instituciones a promover el reconocimiento del valor social de los cuidados y entiendo que este parlamento

en segundo lugar porque como parlamento nos comprometemos a buscar caminos para un desarrollo

y en tercer lugar en esa iniciativa le instábamos al gobierno a realizar una evaluación del modelo y las políticas de atención a los cuidados porque hacer políticas publicas sin datos

este punto el tercero está directamente relacionado con lo que hoy discutimos y con la tarea que le queremos encargar al gobierno vasco

hace más de un año remitir al parlamento para su debate un plan especial para cuatro años que conlleve un cambio de paradigma y concrete políticas de corresponsabilidad y conciliación en este plan se recogerán

universalidad titularidad de las prestaciones y ayudas

por lo que es muy pertinente presentarla sobre todo cuando se ha aprobado y no se ha cumplido

por evaluar lo que se hace y posteriormente elaborar planes para resolver las necesidades y problemas que se presentan pero esto que parece tan de sentido común y de manual tampoco lo comparten los grupos que sostienen al gobierno a pesar de que votaron a favor de este mismo punto durante el debate monográfico

y desafíos demográficos donde dije digo digo diego

lamentablemente hoy no se va a poder conseguir un acuerdo que ya se había aprobado

terrible y es maravilloso ver cómo algunos cambian de chaqueta en función

de no promover ni contemplar esta iniciativa porque no quieren que salga adelante ni se resuelvan los problemas de fondo relacionado con los cuidados para ustedes los cuidados son

unos mundos de yupi metidos en eurodisney o algo así que no saben

konpromiso zehatzak ez dituela bete decía que el balance

que desear mucho que desear cuando ya han transcurrido casi tres años de legislatura y digo esto en primer lugar porque ha habido un retraso en aprobar los instrumentos necesarios para articular medidas de apoyo a las

de apoyo a las familias y eso que el propio lehendakari en el pleno de política general allá por dos mil quince nos dijo que llegaría en breve pues llegó con dos años más de dos años de retraso

se aprobó en verano del año pasado más de dos años y medio de retraso tenemos que decir que las medidas contempladas

que apuntaban una convergencia con la unión europea en el año dos mil veinte tampoco se han cumplido tenemos que decir que también inversiones plurianuales anunciadas a bombo y platillo en precampaña electoral en campaña electoral tampoco se han visto plasmadas en los

de la mano del partido popular tenemos que decir también que ha venido con retraso

que fue el incrementar la ayuda al segundo hijo una anualidad de dos a tres años porque se ha puesto en marcha este verano y eso que fue anunciada señorías a principio de año bueno y luego llegó el gran anuncio el gran anuncio que nos llega precisamente en el debate del pleno monográfico del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho es la prestación económica para las excedencias de paternidad

este anuncio se hace el año pasado hace más de un año todavía está sin implantar y sobre todo

anuncios del gobierno vasco que se quedan en anuncios que llenan portadas de periódico portadas de los informativos y

por lo tanto creo que el gobierno está incumpliendo de forma clara todos sus compromisos los compromisos más importantes en materia

bastante negativo y como decía en mi intervención al principio deja mucho que desear pero es que en esta medida concreta

de paternidad que también se solapa en alguna medida con el permiso de paternidad anunciado por el gobierno socialista por las últimas declaraciones del miembros del gobierno vasco digo que lo vemos con preocupación

no se va a plasmar esta medida este año es que la propia consejera en el debate de presupuestos en la comisión de hacienda cuando se presentaban los presupuestos y veíamos esa consignación de trece millónes para poner en marcha

en esa comparecencia que en el mejor de los casos el decreto correspondiente se aprobaría y que ya veríamos en el mejor de los casos en otoño de dos mil diecinueve

esta cuestión o sea que nos podemos plantear que acabe la legislatura sin que se pueda

fue anunciada a bombo y platillo hace más de un año concretamente el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho

eman genion en este momento a la hora de presentar una enmienda a la propuesta inicial del grupo eh bildu consideramos oportuno introducir los matices o las salvaguardas que en ese momento

oportuno que se tenían que haber introducido en la propuesta que se aprobó con nuestra abstención en el pleno monográfico del año pasado en relación a las políticas

nosotros consideramos importante que se pueda impulsar un plan específico que concrete políticas en el ámbito de la conciliación y de la corresponsabilidad pero siempre que se tenga en cuenta al resto de las instituciones siempre que se tenga en cuenta a eudel y también a todas las asociaciones implicadas

yo creo que a todas las asociaciones implicadas es la enmienda que hemos vuelto a presentar parece ser que no

posibilidad de consenso en relación a las distintas posiciones que hemos plasmado en nuestras enmiendas los grupos por lo tanto nosotros tengo que decir que mantendremos nuestra enmienda en principio si no hay posibilidad de acuerdo tal y como la hemos plasmado en nuestra enmienda de totalidad y respecto enmienda del partido nacionalista vasco y el partido socialista

dice de hecho que se cumpla en cuarto plan y todas las medidas del cuarto plan pero viendo que

en relación a incrementos de ayudas que se contemplaban ha sido incumplido

incumplido claramente el criterio de convergencia con la unión europea pues no tenemos mucha esperanza en que

de incrementar una anualidad de dos a tres años por el segundo hijo se ha implantado con un año y medio de retraso y viendo que la medida estrella

no se va a aprobar ni siquiera este año pues la verdad es que no tenemos mucha

llega con retraso por lo tanto señor lehendakari señora consejera y además aprovechando que está el señor lehendakari presente en este debate no esperaba otra cosa hablando de políticas de familia y sobre todo del gobierno que se erige en el gobierno de las personas un suspenso clamoroso y que veo que es muy difícil

en este momento de la legislatura pero es que además miren el problema lo tenemos ahí o sea tenemos una comunidad autónoma que tiene las tasas de natalidad más baja dos mil quince respecto al año anterior bajo un dos coma ocho por ciento dos mil dieciséis un tres coma dos por ciento dos mil diecisiete un seis coma cuatro por ciento

no solo ya comparativamente con el resto de comunidades autónomas sino con el resto de países de la unión europea irlanda y reino unido uno coma noventa y seis

señor lehendakari señora consejera no sé qué más necesitan para desde luego no apretar el acelerador y desde luego no considerar las políticas de familia y en este caso también como un punto muy importante

no lo entiendo sinceramente no lo entiendo creo que se han dormido en una cuestión clave

esta comunidad autónoma y sobre todo viendo los problemas y las cifras que tenemos por lo tanto no sé cuándo acabará la legislatura pero vemos que viendo la inacción de este gobierno

también menester volver a traer otra interpelación a este parlamento para volver a preguntar a la consejera sobre
las políticas de familia eskerrik asko garrido

sí gracias presidenta hemos debatido en numerosas ocasiones en este parlamento sobre el apoyo

de interpelación presentadas por el grupo popular en el pleno del nueve de marzo del dos mil diecisiete en el dos de noviembre también de ese mismo año y quince de febrero del dos mil dieciocho y la última el siete de febrero del dos mil diecinueve también hemos debatido mociones sobre cuidados

también el grupo elkarrekin podemos hemos debatido en el pleno monográfico del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho donde se acordaron numerosas resoluciones que se han

de debatir en profundidad sobre las medidas a adoptar en apoyo a las familias en nuestra comunidad autónoma de una forma más amplia dentro de este mismo pleno

ya con anterioridad a la moción de febrero del dos mil dieciocho pusimos de manifiesto que la aprobación del documento definitivo se retrasó porque se consideraba que esa estrategia sería deseable que se pusiera en marcha con el

y así se hizo y se firmó el pacto vasco de familias y la infancia en enero del dos mil dieciocho desde junio del dos mil dieciocho con posterioridad al monográfico de familia contamos ya con el cuarto plan de apoyo a las familias dos mil dieciocho dos mil veintidós donde se materializó y el pacto en medidas concretas porque los réditos de las estrategias se consiguen con el paso de los años y eso exige una estrategia global que no cambie cada poco tiempo sino que se mantenga y perdure para que los resultados sean los deseados

y también es importante conseguir ese cambio de cultura y social y ese cambio cultural dentro de las empresas

reiterado en numerosas ocasiones que no podemos basar esa estrategia global sobre políticas cortoplacistas basadas fundamentalmente en aspectos asistencialistas de ayudas a la conciliación sino que por el contrario ha de abarcarse aspectos más amplios debemos de avanzar en el modelo

hay que tener en cuenta que somos la única comunidad autónoma que va ya por el cuarto plan de apoyo a las familias y que además

se han ido destinando más recursos a estas ayudas sociales y se considera además como un derecho subjetivo y universal

tenemos buenos mimbres en la propuesta original que se nos planteó por el grupo

de familias se elabore aparte esta estrategia una estrategia global recogida en el cuarto plan de apoyo a la familia otro plan especial

y que además en el diseño se realice en colaboración con movimientos feministas

y en la transaccional firmada con el grupo elkarrekin podemos se añade además

un colectivo concreto dentro de ese plan el elegido por el grupo elkarrekin podemos para incluir medidas especiales para abordar problemas concretos para familias homoparentales y homomarentales y nosotros no estamos de acuerdo con lo planteado

somos partidarios de estrategias globales que traten todas las necesidades en su conjunto y para todos los colectivos para conseguir cambiar tendencias

y nos sirvan para conseguir los objetivos que perseguimos ustedes plantean y estamos viendo últimamente muchas propuesta similares donde hay un plan global ahora quieren que

un plan especial y que se elaboren planes distintos y específicos para diferentes colectivos y eso no es correcto a nuestro juicio y contar con una estrategia no impide ahondar en medidas que vayan en ayuda a la conciliación y en mejora a la corresponsabilidad porque dentro de dicho plan ese cuarto plan se pone de manifiesto la necesidad de dirigirnos en esta línea

europeo y eso es lo que precisamente este plan pretende conseguir no vemos positivo que aparte ahora se tengan que aprobar planes específicos hoy para un colectivo mañana para otro para otro para otro eso no nos parece seria y es por ello por lo que no hemos apoyado la enmienda transaccional el partido popular en su enmienda a la totalidad también plantea que se elabore un plan especial para cuatro años que concrete políticas de corresponsabilidad y conciliación a impulsar en los próximos años y en la misma línea no nos parece tampoco necesario porque contamos ya con el cuarto plan de apoyo a las familias donde ya están estas cuestiones es por ello por lo que vamos a apoyar nuestra enmienda a la totalidad la enmienda firmada por el partido nacionalista vasco y el partido socialista

donde se insta el parlamento vasco al gobierno vasco en dos cosa a que desarrolle las medidas contempladas en el eje

que inciden en una mejora en la conciliación corresponsable

contra la brecha salarial con el fin de favorecer así un reparto más equitativo de las tareas del cuidado contamos con los mimbres para nosotros los cuidados la conciliación la corresponsabilidad son importantes pero consideramos que ya están recogidos dentro
de este cuarto plan de apoyo a las familias nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

ante la presentación de la proposición no de ley por lo que respecta a las enmiendas presentadas

cuando las evaluaciones hace tiempo que están materializadas con la colaboración de un amplio grupo de personas expertas y académicas

con un amplio consenso también en lo referido a conciliación y corresponsabilidad entre los diversos agentes del sector

el primero de los cuales se realizará una evaluación intermedia en el año dos mil veinte al objeto de actualizar los datos que permiten diagnosticar las principales necesidades

y promover cambios y adaptaciones en la formulación de las actuaciones en caso de que la evaluación así lo aconseje

en torno a contemplar medidas especiales para abordar las problemáticas concretas que afectan a las familias homoparentales y homomarentales tal y como ya he dicho en euskera el propio cuarto plan de familias incluye como principio de actuación entre otros

igualdad de trato y no discriminación pues el plan parte del reconocimiento del profundo proceso del cambio en el que se encuentran inmersas

las trayectorias de la vida familiar y las relaciones intrafamiliares y busca que todas las estructuras familiares cuenten con el mismo grado de reconocimiento y de protección social

por motivos de origen racial étnico o nacional y por orientación o identidad sexual e identidad de género

por otra parte señora garrido en cuanto a su enmienda creo que ya he respondido y probablemente en el segundo turno de palabra todavía lo haré de una manera más específica a la no necesidad específica del plan ante la existencia de los planes y estrategias que tenemos entre manos

de acción para reducir la brecha salarial y la próxima estrategia sobre el cuidado de las personas cuidadoras estando de acuerdo con usted en torno a la necesidad de hacerlo siempre contando con el resto de instituciones eudel agentes sociales y asociaciones implicadas

que de la mano de acuerdos amplios con visión de futuro y de país guzti horren aurrean guk gure zuzenketa aurkeztu genuen

estas son las votaciones del pleno monográfico que realizamos aquí en marzo

es donde debatimos esta propuesta que nosotros acordamos con ustedes y con los miembros del gobierno y dice

sí elkarrekin podemos sí partido socialista sí y abstención del partido popular o sea que usted nos habla de políticas serías

un plan sobre otro plan pero es que usted acordó con nosotros hacer esto incorporarlo al plan de familias usted con el partido nacionalista vasco y con los miembros del gobierno porque no fue de manera unilateral también estaban presentes los miembros del gobierno y vamos a recapitular miren ados gaude diagnostikoan bai

que podían llevar algo así como el gobierno se reserva el derecho a no cumplir con lo acordado y encima decir

el camino que ellos elijan será el mejor para todas pues me parece

muchas de las cosas que hemos hablando aurrekoa esan bezala ba adostasunak eta desadostasunak ditugu

porque algunas políticas que se están aplicando actualmente son perversas para las mujeres y si pedimos evaluarlas es para que detecten todas aquellas perversas para las mujeres y pongan y planteen otras que no lo sean

décadas y es que ustedes los del pnv entre las necesidades de cuidado

y de esa visión y proyecto de país surgen los problemas de conciliación no

para conciliar porque han organizado el mercado laboral como si no existieran los cuidados y porque a las mujeres se nos exige cuidar

la vida de nuestras familias y si no que se lo pregunten a rementeria que él lo tiene muy pero que muy claro y ustedes

ese que rivera pensó que estaba descubriendo para el mundo eso sí ustedes con label vasco promueven políticas de supuesta igualdad que son

las políticas de conciliación desarrolladas por el gobierno vasco hasta el momento

lo dicen y no hacen nada para cambiarlo son una trampa que ustedes perpetuán y consolidan una desigualdad que les beneficia a quienes necesitan trabajadoras precarizadas y promueve que alguien sostenga la reproducción social baratito para las arcas del gobierno vasco y señora sánchez que vayamos por el cuarto

excedencias o abandono del mismo motivadas por el cuidado que todas podemos ver también el informe de impacto

sigue recayendo sobre las mujeres la responsabilidad principal del cuidado de las personas dependientes la brecha de género la tasa de ocupación se incrementa a medida que se va teniendo más descendencia cuando no se tienen hijos o hijas la brecha es de un siete coma dos por ciento mientras que asciende hasta al quince cuando se tienen dos o más hijos o hijas

cuidadas dignamente pues más de lo mismo ayudas económicas pero ninguna intención de poner a esas personas en un lugar de las políticas públicas para que cada persona

que beneficia solo a unos pocos en euskadi señora artolazabal y señores del pnv y del pse

que están en el limbo de la dependencia así que calculen cuántas familias están con serios problemas para conciliar y cuantas trabajadoras domésticas están resolviendo los cuidados

por la falta de respuesta de este gobierno y si nos hablan de estrategia de brecha salarial nos están hablando de un documento que publicaron sin el respaldo del sesenta por ciento de la representación sindical pero que tuvieron el atrevimiento de utilizar sus siglas para aparentar respaldo un documento

porque solo lo deben de ver ustedes porque nosotras y creo que nadie es capaz de encontrarlo y además tienen conflictos laborales por brecha salarial en sectores que son de entera responsabilidad

en todo euskadi que son de su entera responsabilidad las limpiadoras de comisaria y oficinas judiciales llevan ocho meses de huelga por brecha salarial cuándo piensan hacerse responsables

con las medidas y los contratos que ustedes

y el pp se han puesto de acuerdo para aprobar la ley de policía en la que han rechazado a optar medidas para terminar con la brecha salarial

con label vasco y sin nos fijamos en el modelo de familia

hijo hija y seguro que también alguna mascota fotogénica

y también señala la discriminación constante que persiste en el sistema educativo hacia las familias no heteronormativas

familiar señora sánchez sus estrategias globales

heteronormativo y no atender a otras realidades y sus necesidades se llama feminismo liberal y para algunos colectivos

poner mira por poner un ejemplo una pareja de lesbianas con el permiso por paternidad paternidad que

atiende a sus necesidades se lo han planteado en algún momento y si hablamos tal y como ustedes dicen señor urrutia de en el cuarto plan interinstitucional de apoyo a las familias de principios de no discriminación

estamos visibilizando e incluyendo otras realidades a eso le llama usted globalizar pues vaya globalización es muy perversa

sobre las que usted hacen sus planes globales ustedes creen que poniendo un párrafo ya está todo resuelto
ese de no discriminación bla bla bla bla bla bla hay que hacer medidas atendiendo a las necesidades de los diferentes modelos de familias de lo contrario estamos amaitzen joan arana andrea momentu bat mesedez

familias señora sánchez su globalidad es perversa para las minorías

tan solo un año una iniciativa que fue aprobada de forma unánime ustedes la están boicoteando sin pudor

desde luego nosotras lo tenemos claro vamos a seguir trabajando vamos a seguir poniendo los cuidados en el centro del debate parlamentario

una euskadi que sea para todas y para todos y no solo para unos pocos eskerrik asko arana andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

zerbait egiteko arlo honetan la pregunta es por qué hemos tenido que debatir tantas iniciativas en materia de familia por qué sigue siendo necesario debatir tantas iniciativas en materia de política familia y parece ser que en el futuro va a tener seguir siendo necesario traer a este cámara desde luego este partido y este grupo parlamentario si continua la legislatura pues así lo hará

difícil de revertir una tendencia y una situación

muy deficitaria o de un balance muy negativo en relación a las políticas

por una actitud de este gobierno pero bueno si la intención del lehendakari es acabar la legislatura

el balance pésimo no solo que tiene en políticas de familia sino en producción legislativa porque vamos eso son cosas del propio lehendakari pero quiero decir

nada es que ustedes no han hecho nada y no se ría yo creo que este tema es muy serio es que ustedes anunciaron que incrementaban una anualidad de dos a tres años y le ha costado año y medio es que ustedes el año pasado anunciaron la excedencia del permiso por maternidad remunerada y todavía va a acabar el año y no la van a poner en marcha dos medidas señor lehendakari

y por falta de diligencia de aprobar los instrumentos necesarios que den cobertura para que esas medidas se puedan poner en marcha no se han aprobado en el tiempo oportuno y hay muchas cantidades que no se han podido ejecutar en el año previsto señor lehendakari no me diga si esto no es inacción

apatía si esto no es pasividad de un gobierno

es que usted usted nos ha dicho muchísimas veces que es el gobierno de las personas

y perdone que se lo diga así ha dejado a las familias vascas tiradas en una comunidad autónoma

en donde tenemos un problema de envejecimiento de la población con un gasto sanitario y social creciendo

la verdad llevo tres años sobre todo este último año tratando de buscar una razón a esta es que inacción apatía pasividad ya no sé

esencial y que tenía que ser absolutamente prioritaria viendo la situación en la que estamos en euskadi es que luego usted por el otro lado tiene un problema porque si la población en euskadi cada vez más envejecida tenemos más problemas también con la dependencia

es que euskadi no es atractiva tampoco para los jóvenes que deciden irse a estudiarse fuera que está muy bien pero el problema de los jóvenes vascos

a formarse fuera a tener un currículum profesional

ese talento se lo quedan fuera porque no vienen al país vasco porque euskadi está dejando también de ser atractiva para los jóvenes que han nacido en euskadi señor lehendakari

la falta de diligencia de un gobierno en relación a estas políticas es que yo no he coincidido

de la propuesta y de la propuesta de resolución no coincidí y no coincidí por los motivos que he señalado porque nosotros creemos que el consenso

una serie de colectivos determinados pero es que tienen razón es que ustedes han incumplido un compromiso del propio pleno monográfico es que qué credibilidad tiene un gobierno

sus propios compromisos los compromisos que van en su programa de gobierno los compromisos que van en el programa legislativo en el programa legislativo en el calendario legislativo los compromisos que van en los planes que aprueba este gobierno qué credibilidad tiene que ustedes nos digan aquí que van

muchas de ellas en incrementos de ayudas concretas en anualidades concretas están

vamos a ver cuando estábamos en el

el deseo de todos los grupos parlamentarios de esta cámara es que se elaborara

a las familias se elabora ese plan de apoyo a las familias en junio del año pasado se saca ese plan se recogen un montón de medidas dentro

y décimos es que el plan no nos gusta ahora queremos que se hagan

más todavía que no es malo que siempre seguir avanzando es bueno pero claro tenemos un plan recientemente aprobado y ahora queremos un plan para este colectivo mañana vendrá otro y troceamos para otro

globales con estrategias globales que es a lo que yo me refiero y la globalización de un plan donde se recojan las necesidades de diferentes colectivos no es malo y no quiere decir que no se quiera hacer

de los diferentes tipos de familia porque por supuesto

necesidades de unos y otros y desde luego para nosotros es importante

la corresponsabilidad la lucha contra la brecha salarial

mejoras en materia de conciliación y se han adoptado medidas y se han adoptado medidas contra la brecha salarial dentro

pero es que también se nos olvida que en todo este transcurso de tiempo se han ido aprobando otras cosas también a nivel nacional verdad porque aquí

afectan a lo que estamos hablando hoy porque desde el gobierno de españa a primeros de año por parte del gobierno de pedro sánchez con el apoyo de algunos

a adoptar políticas y medidas precisamente en para mejorar diferentes áreas de las que hemos hablado hoy aquí como el permiso de paternidad remunerado

el anuncio de lo que se iba a hacer no existía este decreto aprobado verdad trastocará algo será bueno que se haya aprobado a nivel nacional para todo el mundo sí

al dinero que desde aquí tiene que ir dirigido a eso porque se ha aprobado algo posterior que esta interrelacionado también con eso pues sí

en el país vasco como nosotros y como era nuestro

a nivel nacional y se ha recuperado el decreto a la cotización de los cuidadores no profesionales que ya se está pidiendo

salarial también a principios de año también apoyado por diferentes grupos de esta cámara que van dirigidos a adoptar políticas y medidas para mejorar

para nosotros está muy claro que todas estas políticas todo lo referente a la conciliación

a la lucha contra la brecha salarial es muy importante por eso adoptamos medidas dirigidas precisamente para conseguir mejoras en ese sentido

teníamos como he empezado a decir al principio de mi exposición

que hay que tener que hay que seguir aplicando y por eso nuestra enmienda a la totalidad va dirigida

ahondar precisamente en esas medidas que están recogidas en ese plan por eso nosotros apoyamos nuestra enmienda

y no nos hemos unido a la enmienda transaccional y por eso nosotros vamos a votar a favor de nuestra enmienda y eso no quiere decir que no hagamos políticas en ese sentido porque sí

en dicho pleno monográfico se aprobaron noventa y tres resoluciones setenta y tres están incluidas o contempladas en el plan encontrándose formuladas como principios medidas o valores y varias de las resoluciones tienen su reflejo en los principios rectores del plan

las resoluciones dirigidas a la conciliación a favorecer la situación de las unidades familiares con mayores dificultades o a la atención a la infancia desprotegidas entre otras

hay que señalar que veinte iniciativas no han sido incluidas en este plan por las siguientes razones tres resoluciones porque el contenido recogido en las mismas no son competencia de las administraciones vascas

para incluirlas en un plan y dos que no son una resolución como tal sino que deben ser tomadas como declaraciones del parlamento non dago letra txikia hemen kortajarena andrea

hablaba usted de incapacidad para dialogar

me da la impresión de que no tiene ni idea mismamente la señora kortajarena en su primera intervención ha hecho un somero repaso de toda la evaluación donde están los datos la que si quiere le puedo remitir pero hay una cosa que

me molesta especialmente que me traten con este tonito de superioridad moral

incluso la situación de las mujeres la conciliación la corresponsabilidad etcétera

en euskera abertzale punto pelota y si quiere otro día cuando tenga

lo que eso significa señora garrido hombre

betebeharrak ez dituela bete gobernu honek incumplimiento de las promesas electorales hombre mire yo desde que el señor urkullu por lo menos era presidente el euzkadi buru batzar he asistido a muchos mítines del señor urkullu y aquel día que dijo eso pues debe ser que no asistí pero de todas maneras

estamos en el cuarto y aquella dotación económica que en aquella promesa electoral el señor urkullu mire el actual plan está dotado de mil setecientos millónes por los datos que obran en nuestro

de este gobierno y de los que doscientos ochenta y seis millónes se dedican al tema que hoy

es decir probablemente incluso independientemente de que puede que los plazos del tiempo no se cumplieran independientemente de eso yo creo que con el plan que tenemos entre manos amaitzen joan con el debiéramos seguir trabajando tenemos más que cumplidas incluso aquellas promesas electorales
de las que usted siempre hace tanta referencia eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

ingurumena babestuz eskualdeko garapen sozioekonomikoa iraunkorra posible egiten dugula ayer fue el día internacional del medio ambiente

en nuestra opinión para reforzar el compromiso de este parlamento no solamente con la protección del medioambiente sino con una decisión que se tomó en este mismo parlamento hace ya casi treinta años que fue el de declarar la reserva de la biosfera de urdaibai

naturales sino también sus valores humanos y treinta años después consideramos precisamente por eso que es un buen momento para hablar sobre el desarrollo

que para quienes no lo sepan es el plan de armonización y desarrollo de las actividades socioeconómicas que rigen en una reserva de la biosfera un padas

finalizó en dos mil quince y que se va a comenzar a elaborar el nuevo en este primer semestre según las informaciones que llegan del gobierno

hace ya doce años nuestro grupo considera que urdaibai necesita un padas necesita un plan de desarrollo socioeconómico para

para romper una idea preconcebida y yo diría que incluso maliciosa de que proteger el medio ambiente impide hacer nada en ese lugar que se ha protegido y por otro lado y todavía más importante para revertir

desde hace milenios diría yo y que a día de hoy sufren un declive acusado

desde el año ochenta y nueve que se declaró la reserva hasta diez años después el porcentaje de tierras cultivadas descendió un cincuenta por ciento el porcentaje de animales un cuarenta por ciento cayó solo en diez años desde el año ochenta y seis hasta el dos mil dieciséis

a solo veinte y además estos veinte se dedican a la pesca de las especies con menor valor comercial como por ejemplo el verdel y qué decir de la gestión forestal tenemos un cincuenta por ciento de la superficie arbolada de urdaibai

y lo preocupante no es el pino radiata sino que en menos de quince años los eucaliptus han pasado de un once por ciento a un diecisiete por ciento es decir en menos de quince años tenemos

podría seguir así con la industria y con otros sectores pero creo que lo que nos interesa es centrarnos en el futuro urdaibaik

egindakoa ez da nahikoa izan algo tiene que cambiar para que urdaibai siga siendo un espacio vivo y no

no basta con promover el turismo yo diría que no solamente no es suficiente sino que tampoco es recomendable y no nos meteremos aquí sobre los efectos perniciosos del turismo de masas pero lo que es fundamental lo que es fundamental es recuperar las actividades tradicionales

de otra manera de una manera más sostenible más moderna y que permita mejorar la capacidad de esas actividades tradicionales para adaptarse a los nuevos tiempos en mi interpelación de hace diez días a las consejera tapia

sin su mundo rural y litoral y yo le añadía y tampoco sin su medio ambiente

y yo complemento rural vivo diverso activo y sostenible y para eso hace falta un equilibrio entre proteger y vivir entre el ser humano que vive y la naturaleza que debe ser protegida y comprender que si bien el medio ambiente no es un valor estático tampoco es posible hacer de todo en todos los sitios y es cierto que el medio ambiente no puede ser un jardín pero tampoco se puede entender urdaibai como el jardín que rodea al chalet que hemos construido

para proteger un espacio natural que es importante per se y que lo importante es protegerlo sea cual sea la institución que lo gestione azken finean

eso ya lo decidimos ya lo votamos por unanimidad en este parlamento en esta misma legislatura hace dos años el asunto es cómo desarrollar ese padas con la ayuda de todos los agentes económicos y sociales

el apoyo ciudadano y reforzando también el compromiso institucional

ese es el objeto de nuestra moción hoy y ese debería de ser el espíritu de la decisión que adoptase este parlamento como hoy

gracias presidenta y buenos días a todos la iniciativa que hoy nos trae el señor becerra de manos de elkarrekin podemos

sino también sobre la concepción que cada uno de los grupos aquí presentes tenemos del futuro de nuestra sociedad creo que todos los aquí presentes

debe realizarse sobre la base de un equilibrio medido y responsable

nuestro patrimonio natural la conservación de nuestros valores culturales y el desarrollo socioeconómico de un país vasco prospero y donde el bienestar futuro del conjunto de la sociedad se vea garantizado ante amenazas tan reales como el cambio climático

en el marco de las reservas de la biosfera con tres objetivos claramente definidos uno

otro el desarrollo sostenible y el apoyo logístico referido al conocimiento científico y la educación para la sostenibilidad

un laboratorio de experiencias para conseguir el equilibrio entre la conservación y el desarrollo sostenible en definitiva para mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en la zona el departamento del señor arriola desde el principio de esta legislatura

se han hecho muchas cosas y lejos de ser un parque temático y un lugar únicamente vinculado al turismo la realidad es clara antes hace unos años

se intentó un proceso de participación en búsqueda del consenso pero es verdad que no se logró

por parte de personas y organismos tan diferentes como una asociación forestalista una organización medioambiental y un particular contenciosos

y sobre todo nos topamos con una mala imagen para algunas personas dentro

es verdad ser vista como un instrumento generador de bienestar y riqueza y sí como una oficina que algunos entendían más administrativa desde el gobierno vasco se ha afrontado el reto

y búsqueda de consenso social y político en algo que se presuponía complicado y en este sentido me gustaría señalar que en esta cámara

una proposición de ley relativa a la suspensión de la modificación que fue trasladada de inmediato al seno de la reserva adoptándose acuerdo del pleno del patronato en sesión del veintiocho de junio y promulgando la orden del catorce de julio de dos mil diecisiete del consejero del medio ambiente planificación territorial y vivienda

iniciar los trámites de modificación del prug de la biosfera por tanto cumpliendo con el mandato parlamentario desde entonces se ha trabajado realizando una serie de informes

urbanístico y técnico de la situación real de la reserva y su ámbito de responsabilidad

con un máximo consenso en el pleno del patronato del día tres de mayo y que actualmente está en tramitación administrativa por tanto este gobierno está trabajando en el cumplimiento y en los compromisos adquiridos señor becerra usted entraba en su moción y en su momento en la interpelación que le precedía

y tal y como se le contesto por escrito previamente me gustaría destacar algunas acciones que ya se han puesto en marcha respecto al objetivo estratégico un espacio rural desarrollado en su multifuncionalidad en la producción y comercialización la formación y el empleo el papel de la mujer y en general todo lo que afecta a la calidad de vida

este cuatro de junio se aprobó el proyecto de decreto por el que se regulan las subvenciones destinadas a la compensación económica por la pérdida de rentabilidad financiera en la reserva de la biosfera de urdaibai

adecuada por medio de acuerdos de custodia o decreto de compensaciones proyecto que en definitiva viene a fomentar el cambio de especies alóctonas o de crecimiento rápido

en la repoblación para aprovechamiento o restauración es decir este es un acuerdo de esta misma semana respecto a disponer de un sector turístico que avance en gestión estructuración y promoción exterior

el servicio de la reserva de la biosfera de urdaibai de la mano de la asociación de desarrollo rural

han emprendido el camino para su adhesión como primer espacio protegido de euskadi a la carta europea de turismo sostenible no es solo

que existe esta carta europea de turismo sostenible que creo que es importante todo esto a través de una mesa técnica y de un foro permanente de participación

respecto a la optimización de infraestructuras hacia la atracción de actividades que estén en consonancia

y que integre con otras zonas se ha puesto en marcha la ejecución del último tramo del itinerario peatonal que también era algo demandado por los vecinos

y ya se ha puesto en marcha la realización del diagnóstico y las propuestas de trabajo que todos esperamos que concluyan a finales de dos mil veinte cumpliendo con los compromisos creemos que hay que poner en valor la importancia de la participación pública en estos procesos pero nos gustaría poner también en valor el papel del propio patronato de la reserva como el del consejo de cooperación de la reserva porque ya la ley de urdaibai la que usted nos hablaba

creo este patronato como un órgano rector de la reserva integrado por representantes del parlamento vasco

de la administración del estado así como representantes del programa hombre y biosfera de la unesco de la universidad del país vasco representantes y asociaciones ecologistas

y de asociaciones de euskadi con una trayectoria acreditada en el estudio y protección del medio ambiente y el propio director conservador de la reserva

en lo que tiene que ver con la reserva yo creo que está más que acreditado que efectivamente está viendo participación es más mediante el decreto ciento sesenta y cuatro barra mil novecientos noventa y cinco se creó el consejo de cooperación de la reserva de la biosfera de urdaibai

de sectores sociales con incidencia en el territorio de la reserva de la biosfera porque se entendía que era importante la implicación no solo de las instituciones implicadas que por supuesto deben estar sino también de quienes conocen y trabajan en el ámbito el que estamos hablando también aquí se ha querido actuar y potenciar el papel participativo de todos los agentes sociales de la comarca con la incorporación de la sociedad aranzadi que cuenta también con ayuda del departamento de medio ambiente además de todo ello y como ya hemos puesto

en torno a foros o mesas porque el departamento así lo cree

para incorporar todas las voces de la comarca que nos permitan disponer de un nuevo

eficaz además de esto se está trabajando en el plan para la interpretación investigación capacitación y educación para la sostenibilidad donde el papel de la comunidad científica e investigadora es crucial para enriquecer la gestión y la toma de decisiones

por tanto desde el grupo socialista creemos que queda claro el interés y compromiso de este gobierno con la reserva en esta cámara se ha trabajado mucho en dotarla de lo que requería

y ello creo que podríamos interpretar que se está trabajando y ocupando en este tema

que es quien proponía la iniciativa original y desde luego nos reafirmamos

reconociendo que todavía quedan temas pendientes pero también reconociendo que se ha trabajado para continuar avanzando con aspectos que es verdad
que tenían ciertas carencias nada más y muchas gracias eskerrik asko rojo andrea euzkal abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

señor becerra porque usted menciona la clave de la sostenibilidad que es sobre el que versa

la sostenibilidad tiene o debe tener tres patas tiene la clave de sostenibilidad medioambiental que es

dos otras partes dos pilares añadidos que son sostenibilidad y sostenibilidad social porque estamos hablando de políticas públicas y la mejor forma de garantizar la pervivencia en el tiempo de las políticas públicas es que detrás tengan un presupuesto que las acompañe y ocurre

no hemos dado con esa fórmula que conjuga las tres patas

no compatibiliza aun del todo el respeto al medio ambiente con el desarrollo económico con un crecimiento económico y por tanto

que la conflictividad en el pasado se deba a la falta de mesura de anteriores gobiernos sino más bien primero a que es un conflicto en parte también politizado esto yo creo que hay que

y en segundo lugar porque es una fórmula que aún no hemos encontrado necesitamos encontrarla no hablamos de que haya quince o veinte responsables políticos

asoma como un espantajo sino que

tecnologías que tendrán que venir y tendencias globales que tendremos que aprovechar por ejemplo

en el turismo en el sector agroforestal etcétera pero yo creo que los vascos podemos dar el do de pecho en esta materia porque ya fuimos hace fuimos capaces hace sesenta años

y sigue siendo absolutamente rompedor como era el de las cooperativas de mondragón que era un modelo que no existía previamente basado en valores basado en nuestra sociedad civil en la red que tenemos fuerte aún

dos de los tres pilares de la sostenibilidad que era sostenibilidad económica y sostenibilidad social y fue y ha sido y está siendo aún y lo será en el futuro un modelo este sí que revoluciona y que cambia nuestra forma de vida el padas ha

veinte años yo he podido leer en estos últimos días un libro que habla editado en el noventa y nueve de un taller participativo

azpitik gora ekartzea y hay una segunda forma de afrontar el tema que es un tanto

el palo y la defensiva es hay dos formas de enfocarlo la primera es anegar con un aluvión de subvenciones todo el tejido productivo de urdaibai

se podía hacer tenemos una población de dos millónes cien mil una cierta salud económica se podía

porque si queremos un modelo a exportar al resto de euskadi al resto del mundo que sea referente

no nos sirve de nada y en segundo lugar es asfixiando legalmente cualquier tipo de iniciativa privada pasándonos un poquitín de frenada

de titularidad privada sí o sí tenemos que tener en cuenta que la iniciativa privada no florece

hay que promover unas condiciones en las cuales las iniciativas puedan salir adelante y las personas puedan llevar

sin tener que salir fuera desde nuestro grupo seguiremos trabajando hasta dar con ese equilibrio tendrán que venir posiblemente también nuevas tecnologías que

económica y medioambiental los tres pilares que he mencionado al principio equilibrio entre el palo

en un referente para el mundo como ya lo fue y ya lo está siendo nuestro sistema cooperativo único en el mundo y porque queremos que sean los habitantes de urdaibai los primeros en disfrutar de esa

muchas gracias señora presidenta yo la verdad es que no pensaba intervenir mucho porque

vi la enmienda del gobierno que decían no enmendamos

mucho más bonito y dije bueno supongo que nos pondremos de acuerdo todos y diremos

señor becerra en el discurso que nos ha hecho le diré que

pero si usted rasca un poco solo un poco si mira debajo del agua

hace treinta años antes de que se aprobara la ley de la reserva de la biosfera

sin ecologistas no había ecologistas en acción

se organizaba bastante bien y a la gente le pareció tan bueno

en los últimos diez años en la playa de toña está prohibido el baño por contaminación digo por comentar porque podemos hablar si rascamos un poco en tierra la red de saneamiento famosa que llevamos bueno lo del ave es una broma el retraso del ave

cuántos años llevamos veinte veinticinco treinta y ahí sigue se echa en portuondo allí debajo del camping sale allí

se aprovecha cuando baja la marea para que lo lleve fuera claro desarrollo

y social sostenible el desarrollo yo no lo veo por ningún lado sostenible primero tendría que haber desarrollo

el desarrollo yo no lo veo por ningún lado quizás el único desarrollo que he visto es que

se hiciera hace unos veinte años mercante para cuatro barcos que van allí

hasta amorebieta no sé si es

desde mi punto de vista y desde nuestro punto de vista

desarrollo sostenible hay que transformar las materias primas

del sector de la madera que quería ampliar funcionaba bien

quería ampliar no se le dejó se tuvo que ir cerró transformaba materias primas

dice hay que volver a las actividades tradicionales por ejemplo astilleros

no es que ya se prohíbe dragar y ya no pueden salir barcos pues ya no hay astillero en murueta

hace dos mil años se dragaba en esa ría y los romanos subían

ya no hay astilleros las transformadoras de la madera se van

mire le puedo decir también actuaciones de los ecologistas que además crearon puestos de trabajo

hace diez o doce años de arena para recuperar unas dunas que ellos

pero gracias a dios el mar se lo llevó tardó quince años

turismo como usted dice esos van a rocadragón allí hacen las colas

sostenible pues mire le voy a decir ecológicamente está peor que hace treinta años

de las cuberteras o de las armeras y todo aquello o

sí le puedo decir que es que no recuerdo que se haya abierto ninguna veo que se siguen yendo empresas rentables

pregúnteles dónde van dónde trabajan esto es desarrollo sostenible no ahora bien usted nos dice urdaibai sigue vivo

pero se está muriendo se está muriendo

y la ría cada vez tiene más arena sabe usted

extraña pero habitual en su momento hoy solo se pueden amarrar en las cuerdas de las embarcaciones y en las boyas que allí hay porque las peñas que había antes están todas cubiertas de arena y si sigue así

una gran playa que cierre todo desde laida hasta laidatxu

contaminación no hay desagües y no hay trabajo ahora

eta esaten zuen hau hitzez hitz el parlamento insta al gobierno a concretar los retos actuales de la reserva en los ámbitos económicos social y medio ambiental y cultural

contemplado en la ley utilizando para ello indicadores objetivos y consensuados jaitsi da hemen

ba beno rajoy katalanen inguruan esaten zuen bezala el gobierno hace cosas el gobierno hace cosas

vamos a abrir el debate real que necesita esta reserva esatea baina bi urte beranduago ez da bidezkoa konpromisoak

yo he dicho que es valioso valioso y que ese valor no se está sabiendo aprovechar he sido el primero que he dicho en esta tribuna que no va bien económicamente ahora lo que me faltaba por oír es que la culpa fuera de los ecologistas

señor damborenea cuándo han gobernado los ecologistas en la diputación de bizkaia en el gobierno vasco

si urdaibai no tiene saneamiento es en parte

ya desde la época de aznar y antes también y antes también

ni lo ha puesto costas ni lo puso ura en su momento y veinte años después se empiezan a hacer las cosas

es en buena parte por algunos políticos del pp otros no porque el señor aldecoa

defendió muchas veces a urdaibai con mucho más entusiasmo

pero bueno claro que se han destruido empresas pero por qué no dice usted porqué se han destruido inama no se pudo ampliar pero inama había pedido los terrenos de amorebieta de boroa que luego

inama no quería seguir en muxica prefería ir a boroa a amorebieta si no siguió

a unos terrenos más amplios eso lo sabe usted igual que lo sé yo y hay astilleros

astilleros de murueta sigue en murueta haciendo barcos hay astilleros y

cuando se draga una ría sucede que a veces el problema no es los barcos que se dejan de construir sino que desaparece una ola la famosa ola izquierda de mundaka que es la única ola izquierda del mundo que quieren surfear todos los surfistas que vienen a mundaka y el drama del dragado de urdaibai de la ría de urdaibai

sino que todos los surferos que vienen a dejar el dinero a mundaka se van a otro sitio como a usted le gusta decir como a usted le gusta decir y yo es cierto

parte hartze egin behar den dice el señor arruabarrena que hay problemas

yo abogaría también por los del urbanismo expansivo el quinto sector que usted no ha mencionado yo no sé si usted se coloca en los de urbanismo expansivo pero también son un problema también son un problema

es cierto me he referido en mi intervención a que no se puede hacer de todo en todos los sitios lo cual no quiere decir que no tenga que existir una flexibilidad

lo han hecho ahora resulta que el pino radiata está enfermo es culpa de los ecologistas señor damborenea que estén enfermos los pinos claro si cuando usted hace una gestión forestal inadecuada y luego vamos al eucalipto y luego diremos que se nos secan las fuentes verdad que se nos secan las fuentes que teníamos al lado del caserío

que el desarrollo sostenible que no se ha hecho y precisamente porque no se ha hecho quizás estemos en esta situación ahora desarrollo sostenible tiene que ir con el compromiso de todos yo lo que le diría a la señora rojo es hay que resaltar el papel del patronato cierto pero en el patronato están todas las instituciones el asunto es con qué talante van las instituciones a ese patronato

de impulsar o es un talante de frenar y quizás por ahí viene el mayor problema gracias eskerrik asko becerra jauna

hablaba el señor becerra en su primera intervención y además ha hecho alguna mención el señor otero

yo creo que si de algo está claro porque además es un tema que siempre la portavoz en mi grupo he sido yo creo el grupo socialista ha estado en todos los acuerdos que tienen que ver

en todos y en algunos con un papel determinante y le contestaré al señor damborenea red de saneamiento es verdad es verdad lo que usted ha dicho es verdad que hay problemas de contaminación y yo creo que quienes hace creo que fue la legislatura pasada asistimos a una visita

evidencias pero a partir de ahí habrá que reconocer la inversión económica que ha hecho este gobierno en lo que tiene que ver con la red de saneamiento se están cumpliendo todas las fases

finalizó la fase más decisiva en lo que tenía que ver con el saneamiento de urdaibai podemos hablar de millónes de euros

más los treinta y cinco millónes de euros que ha ido invirtiendo el gobierno vasco desde el año dos mil tres por lo tanto cosas pendientes sí necesidad de seguir actuando sí pero hombre habrá también que reconocer lo que sí que se ha hecho y nos decía creo que ha sido el señor otero que el gobierno viene aquí a decir que hace cosas es que es verdad

creo que he explicado en mi primera intervención todas y cada una de las cosas que este gobierno

ha reconocido el compromiso ha reconocido que va a trabajar en la participación porque ya se está haciendo y se habla de descoordinación en instituciones pero si están todas las instituciones implicadas además de los que no forman parte de las instituciones trabajando para que esto se lleve a cabo hay que reconocer

sí creo que lo he dicho en mi primera intervención pero creo también que es justo reconocer

se ha puesto primero a cumplir con lo que tiene que ver con las inversiones económicas y se ha puesto a trabajar con lo que este parlamento le ha pedido unas veces por unanimidad y otras veces no por tanta unanimidad pero se está trabajando en ello y creo que sería necesario reconocerlo nos hablaban de un compromiso de participación es que se está haciendo nos decía el señor otero que no hablamos de plazos pero cómo que no si hay un compromiso

para la realización de un diagnostico y he dicho que en el año dos mil veinte se pretende que este cumplido cómo que no se habla de plazos cómo que no se habla de que hablamos

hombre yo creo que cuando se ha llegado a un acuerdo con el señor becerra es primero porque el gobierno vasco entendía y entiende que es un tema que se necesita a acuerdos entre todos porque aparte la comarca es una comarca muy plural con la que yo creo que se ha trabajado bien y creo que son capaces de reconocer los compromisos adquiridos

es verdad que es muchas veces difícil llegar a acuerdos cuando todas las instituciones implicadas no siempre son del mismo color y no siempre la culpa viene de parte de los mismos o la responsabilidad no hablemos de culpa pero en lo que tiene que ver con la responsabilidad del partido socialista de euskadi

unas veces en la oposición y hoy en el gobierno creo que alguno sí hemos hecho bien las cosas y nunca hemos cambiado de opinión y desde luego esta parlamentaria si no vayamos a las hemerotecas

estaba eh bildu también detrás creo que es justo reconocer también cuando algunos
apostamos por unos temas y no dejamos de apostar en función de si estamos en el gobierno o en la oposición nada más y muchas gracias eskerrik asko rojo

el señor damborenea el tema del saneamiento que es uno de estos casos el primero en el cual

yo creo que en primer lugar hay que reconocer que aunque la carita

evaluación digamos gráfica a pesar de que la carita está

ni triste está en ese estado intermedio es cierto y es justo reconocer que en los últimos quince años han invertido ochenta y cinco millónes de euros

una cierta dispersión geográfica y es una comarca grande pero

destinado ochenta y cinco millónes de euros cierto también es que quedan otros

invertir pero en los cambios que se van a dar con la incorporación de

posiblemente se puedan dar más deprisa desde una gestión más eficiente desde una estructura con más recursos una vez

y señor damborenea en este sentido yo comparto sinceramente su preocupación por la deriva del tejido productivo en la comarca de busturialdea pero sí le pediría una cierta coherencia con los discursos anteriores y con la forma de proceder

y precisamente no para hacerlo más flexible sino para hacerlo aún más rígido por tanto tenemos una cierta sintonía en este tema en el futuro espero debatir con usted y llegar a acuerdos con usted porque seguramente

que con su contraparte verdad que no me está escuchando y por último señor becerra ha hecho usted un planteamiento un poquitín tramposo dice y cuándo han gobernado

mire no han gobernado nunca pero los conservacionistas porque yo hago una diferencia

conservacionistas el que no quiere tocar el medio ambiente y en un área

y con industria no de ahora desde hace dos mil años lo ha dicho el señor damborenea

no se puede dejar intacto sí la zona núcleo si la zona de valor de más valor medio ambiental pero el resto

claro que hay que tocarla y ahí no hay ecologistas muchas veces hay conservacionistas que lo que hacen es

y esto se ha dado además de la politización del discurso y de las estrategias en la zona que yo he denunciado en mi primera intervención nosotros nos sentimos cómodos

cuatro años en la interpelación la señora tapia mencionaba las ciento setenta y siete medidas la potenciación del suelo industrial sobre todo redensificación

el puerto de bermeo la conexión viaria que es un proyecto también pendiente

financiación del exterior porque son cantidades ingentes que es complicado hacerlo en los próximos cuatro años la renovación del mercado de gernika la modernización de la flota de bajura

que habrá que ir haciendo una por una con mucho trabajo y desde luego en aras de encontrar esa formulación que aún no hemos encontrado y que servirá en el futuro estamos convencidos de referente para el resto de euskadi y

señor becerra una cosa son ecologistas serios y otra ecologistas

que van diciendo a los demás lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer pero luego ellos allí por si acaso no se quedan a vivir

dice cuándo han gobernado los ecologistas oiga desde que se creó el patronato de urdaibai

desde ese día hace treinta años están en el gobierno del patronato de urdaibai así que a mí no me venga con cuentos se le ofreció ir a boroa

eso está fuera de urdaibai ah claro da igual claro pero estamos hablando

hay que trabajar fuera de urdaibai e inama no quería ir ahí inama quería estar en urdaibai ampliar en urdaibai pero donde estaba no cabía

y no se le dio en urdaibai se le dijo si quieres te vas a boroa que no olvídese del y los coches que esto fue mucho antes

por favor que es de lo que estamos hablando desde el principio aquí se plantea no no para trabajar fuera

de verdad hablamos de desarrollo sostenible pues desarrollo empieza por desarrollo

bueno me dice que el dragado de la ría se carga la ola de mundaka oiga que yo sepa la ola de mundaka ha existido toda la vida

pero qué argumentos ecologistas compra usted a quién

y el saneamiento si no la señora rojo y el señor arruabarrena yo les reconozco que se están haciendo muchas cosas pero oiga fíjese

hace quince años se ordena clausurar los pozos sépticos de las casas para conectarlo a una red que no estaba terminada sino que estaba en vías de hacerse vale y a partir de ahí se vierte en la ría

estas obras son competencia vasca no son del estado son vascas

le cargaron algunas del alto nervión que era competencia vasca para que lo declararan de interés general y lo pague el estado no confundamos no confundamos eh y si usted es tan ecologista lo primero que le tendría que preocupar es

digo yo digo yo porque no se lo he oído

yo le digo que va mal no es que no va bien va mal

debajo del agua y encima del agua en cualquier caso

de que yo le vaya a negar la voluntad que haya tenido usted o la voluntad que haya tenido el partido socialista yo lo que digo es que

de esta legislatura que estuvimos debatiendo sobre el tema durante toda la primera que hace ya dos años que se aprobó la enmienda transaccionada con ustedes y que dos años después no tenemos nada encima de la mesa y esto se une con el tema

del dos mil siete y el señor arruabarrena me ha afeado que haya utilizado algunos datos de lo que salía ahí

que no he dicho y se me decía que desde el año dos mil siete cuando se hizo la evaluación a hoy han mejorado cosas una vez más muy bien

en el que se podía medir se podía cuantificar qué es lo que se había avanzado y en qué no se había avanzado y qué es lo que hacía falta dónde está

no me vale decir que han mejorado cosas esto es otra vez el chiste de rajoy de el gobierno hace cosas los gobiernos desde el dos mil siete hasta hoy han hecho cosas lo que queremos saber es cuáles cuántas qué porcentaje de implementación

eso en dinero y en tiempo lo que no se puede hacer es dar por bueno el plan que dice que tiene el señor arriola cuando la respuesta exacta es que está previsto comenzar el diagnóstico y las propuestas del nuevo padas a mediados del diecinueve y finalizar a finales de dos mil veinte

y además decir que son unas fechas aproximadas ya que los plazos dependen de los acuerdos que se alcancen en el pleno del patronato es decir insisto no tenemos evaluación no sabemos cómo está el nivel de desarrollo socioeconómico

de aquella estrategia de desarrollo sostenible que se intentó implementar en el año dos mil nueve sabemos que no se han puesto las cosas en marcha que las provisiones económicas que hacían falta no han llegado y que en esta legislatura no vamos a tener un programa de desarrollo socioeconómico de urdaibai eso es lo que queda claro en las respuestas del gobierno después de lo que han dicho ustedes

hará cosas que lo que se pidió hace dos años y se acordó aquí entre todos no se va a hacer yo creo que a estas alturas es evidente y en este sentido es momento

agradeciendo la labor que realizan todas las organizaciones asociaciones que trabajan en este ámbito en el ámbito del cáncer infantil no solo la labor sino también

que nos han trasladado sus aportaciones acerca de la realidad dura del tratamiento de los niños con cáncer pero a la vez esa realidad se afronta con unas grandes dosis de ilusión

con la fuerza de esos niños y que trasmiten los niños y niñas en superar

diagnosticado yo quiero citar aquí también para empezar esta intervención expresamente a las asociaciones de euskadi

a aspanafoa aspanovas y aspanogi las asociaciones

históricos tenemos una estrategia nacional del cáncer que ya nos habla de una línea estratégica específica para la asistencia de la infancia y la adolescencia tenemos recientemente aprobado en euskadi el plan oncológico de euskadi dos mil dieciocho dos mil veintitrés que define ámbitos de actuación en la atención oncológica y el objetivo de este plan es aumentar la supervivencia obtener

mayores tasas de curación tasas más altas y mejorar la calidad de vida de los supervivientes hay que decir que además

de los diferentes cánceres porque indudablemente la ciencia avanza y sobre todo quiero destacar pues la cifra de supervivencia en

infantiles que está casi en el ochenta por ciento y sobre todo que es prácticamente total

ciertos tumores este plan hace referencia a la atención de los pacientes pediátricos diagnosticados con cáncer y

de realizar un enfoque multidisciplinar que incluya distintos aspectos como son aspectos sanitarios psicológicos sociales y educativos

prevención posible pero hay factores que inciden claramente en su curación y en la supervivencia que es un diagnostico precoz un diagnóstico temprano y un tratamiento

en las correspondientes unidades asistenciales a los niños con cáncer en euskadi se les da esa atención en dos centros de referencia

que tienen unas estructuras organizativas con unas características específicas por eso son hospitales de referencia yo creo también aquí hacer

que día a día trabajan en estas unidades y que tratan de curar a estos niños y que también hacen tratan de hacer

el tratamiento y sobre todo porque nos consta que son unos excelentes

la evidencia científica en oncología pediátrica también nos dice que los hospitales con mayor volumen de actividad y más especializados son los que tienen mayores posibilidades de éxito

a los niños como decía en el plan oncológico en el objetivo veintiséis se dice que hay que avanzar el plan recientemente aprobado en la mejora

adolescentes a través de equipos profesionales orientados a dar esa atención como decía integral integrada coordinada centralizada en estos dos hospitales pero que actúan en red pero sí que hemos detectado y además hemos tenido ocasión

como en estas asociaciones ya desde hace muchos años pues hemos tenido comparecencias en este parlamento

especificas en relación a ciertas carencias o ciertas deficiencias que actualmente pueden presentar

estas unidades en relación a determinados espacios que se han quedado pequeños y que en algunos momentos también pues la dotación de personal puede ser insuficiente yo quiero resaltar un dato que es la unidad

universitario de cruces de este centro de referencia abierta en el año ochenta y nueve

pero que actualmente se atienden ochenta y dos nuevos diagnósticos más diez recaídas por lo tanto estamos hablando de noventa y dos niños que son atendidos

de niños que demandan su atención ya solo en este hospital por lo tanto yo creo que es lógico que se puedan redimensionar tanto los espacios como las plantillas en relación a los profesionales que pueden atender

niños si fuese en este caso necesario cuando hemos hablado con las asociaciones nos han trasladado carencias en los hospitales de día en las áreas de consulta en la salas de espera en las salas de descanso en las zonas de reuniones para personal sanitario no me voy a

porque está en las comparecencias está en las transcripciones nuevamente son muy ilustrativas de las demandas y de la situación de estas

actualmente quiero también hacer una referencia a la situación de los niños con cáncer de álava que obviamente son atendidos en cruces como no podía ser de

a cruces para hacer los tratamientos y las sesiones de los tratamientos correspondientes las pruebas y los controles y sí que nos han trasladado

asistencial y que se realizara esto con absolutas garantías como no puede ser de otra forma y aquí además tendrán una voz

los profesionales que trabajan con estos niños en ver la viabilidad de que algunas de estas pruebas previas al tratamiento correspondiente

a cruces se pudieran realizar en vitoria me consta que este tema además por parte del departamento se está haciendo ya alguna actuación

agradecer la sensibilidad del departamento y está aquí presente la consejera con esta cuestión

que solicitábamos en nuestra propuesta inicial planteada y la propuesta esta propuesta concreta va en el segundo punto estudiar la posibilidad de que algunos análisis previos

en vitoria con absolutas garantías y por otra parte en el punto uno hablábamos de la realización de un plan o actuaciones de mejora tanto en los hospitales universitarios de referencia de cruces y donostia

aprobatuko duzuela esta iniciativa no pretende sino

estamos hablando de una atención compleja una atención que tiene que ser integral

el impacto que supone en las familias la decisión de que un niño es diagnosticado de cáncer y también no solo el impacto que está ahí y obviamente eso conlleva que se tenga que dar esa atención integral y desde

aspectos también la relevancia de los padres en todo el proceso de curación acompañando a sus hijos en el acceso a la información y por eso

señalar en esta intervención la importancia de ese apoyo psicológico y social en todo el proceso del tratamiento yo me voy a quedar ahí porque creo que es un acuerdo razonable como decía quiero agradecer a los grupos que apoyan al gobierno a la señora otalora y a la señora rojo

posibilitar un acuerdo que creo que supone un avance y creo que además es un motivo también más

profundizar en esas líneas del propio plan oncológico y avanzar en las posibilidades de curación de cáncer en este caso el cáncer infantil y como decía también a elkarrekin podemos y a bildu que además desde el principio

y no la enmendaron por lo tanto me quedo aquí eta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

gracias presidenta y buenos días otra vez a todos y a todas el asunto que hoy nos trae la señora garrido es uno de esos asuntos en los que el acuerdo es casi una obligación para los diferentes grupos parlamentarios no tanto el

que después de haber escuchado en comparecencia a los representantes de las asociaciones de gipuzkoa y de bizkaia incluso algunos grupos parlamentarios nos reunimos en las propias dependencias del grupo

de que efectivamente todavía hay cosas en las que podemos mejorar unas más fáciles que otras unas con una dotación económica o con modificaciones de

del gobierno de poder seguir humanizando lo que es

como decía todos compartimos la preocupación por la atención a los pacientes pediátricos con cáncer en euskadi y desde luego el reconocimiento como decía la señora garrido a las organizaciones y asociaciones que trabajan de la mano de las familias de estos niños y niñas

realizan su labor de una forma también reconocida por los afectados

que desde su punto de vista y con un tono realmente generoso plantearon aquellas carencias que consideran urgentes resolver algunas que ellos entendían que venían de

pronunciándose de una forma más clara reconocían el valor de los profesionales de osakidetza y valoran la atención que reciben los niños y niñas

como decía humanizar la enfermedad es fundamental para que el recorrido durante el tratamiento sea más llevadero y sí que creo que y el gobierno vasco comparten estas peticiones y desde luego

que entienden que se están poniendo sobre la mesa para poder ser solventadas y que algunas ya estaban reconocidas en el plan oncológico de euskadi que ya se presentó en sede parlamentaria aunque los casos del cáncer en menores son pocos aunque al mismo tiempo son demasiados la enfermedad tiene una gran relevancia a nivel de la salud pública para estas edades si miramos los datos de toda españa el cáncer infantil es la segunda causa

en las últimas décadas más del setenta y cinco por ciento de los niños y adolescentes tratados de cáncer pueden superar esta enfermedad

en la justificación la señora garrido ya nos habla del plan oncológico dos mil dieciocho dos mil veintitrés del modelo asistencial de la atención y como decía al principio

compartimos la necesidad de seguir actuando en este tema de ese plan y del objetivo número veintiséis del mismo ya hablábamos en nuestra enmienda y es uno de los puntos acordados con el grupo proponente

podemos decir que en el caso del hospital de cruces en los últimos años se ha ampliado el número de camas se han habilitado espacios específicos para las familias recientemente se han llevado a cabo reformas en los baños para las familias

humanizar estos espacios se han mejorado también espacios para los profesionales de los que también hablaban

y además también se han llevado a cabo mejoras en la atención a domicilio pediátrica al mismo tiempo que para este verano también están previstas algunas obras de mejora en las habitaciones y en el hospital de donosti que es verdad que es diferente cómo se trata porque allí están divididos en tres pisos diferentes

a los niños y niñas y recientemente se han llevado a cabo también reformas en habitaciones como decía la señora garrido

pruebas previas a tener que acudir a los hospitales de cruces y en esta línea también está el gobierno vasco como ya todos conocemos y como nos ha explicado el grupo popular

se continuará trabajando para mejorar lo que se considere necesario y en todo aquello que tiene que ver con los recursos humanos el plan oncológico ya habla de este asunto al mismo tiempo que de la atención integral y de la calidad que todos perseguimos y por lo que se trabaja

por tanto creo que es importante haber llegado a este acuerdo es verdad que las demandas eran muy concretas y abarcaban desde la parte económica la parte humanitaria

cosas que para algunos grupos parlamentarios nos parecen mucho más fáciles de llevar a cabo pero que desde luego entendemos que el departamento de salud

la enfermedad reconocer desde aquí la intervención que hicieron las organizaciones en el pleno en aquella comparecencia porque es verdad que cuando se viven situaciones tan dramáticas como vivir la enfermedad de un niño con un cáncer creo que el tono fue de reconocer fueron absolutamente

comprendían la dificultad muchas veces que desde la administración se puedan llevar a cabo algunas de las peticiones que planteaban por tanto como digo celebrar el acuerdo y desde luego esperar que poco a poco se vaya mejorando en las demandas que en este caso planteaban las organizaciones y otras que el propio plan oncológico que ha realizado el gobierno reconocía
desde su propia redacción por tanto nada más y muchas gracias eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak otalora anderea zurea da hitza

presidente andrea egun on guztioi debatimos hoy sobre una cuestión que a todos y a todas nos sensibiliza mucho ya que estamos hablando de una enfermedad

sin duda parece que todos los esfuerzos que se hagan nos resultan insuficientes qué decir cuando nos ponemos delante de aitas y amas y nos trasladan sus vivencias y experiencias respecto a

y como resultado de este compromiso y alienado con los principios del plan de salud se ha elaborado el plan oncológico de euskadi dos mil dieciocho dos mil veintitrés que pone en el centro del sistema al paciente y a sus necesidades a lo largo de todo el proceso de su enfermedad

como las emocionales dándole o al menos intentando darle una respuesta integral desde un punto de vista multidisciplinar plan honek gainera

lo cual pone de relieve el grado de preocupación y atención que desde el departamento de salud se da a estos pacientes

propia realidad de estos pacientes niños niñas y adolescentes se entiende que necesitan de un enfoque diferenciado tanto por lo que hace referencia a su tratamiento como

adecuaciones estructurales en la atención oncológica pediátrica de manera que estos pacientes y estas pacientes son atendidos en dos unidades de referencia

y de donostia con el objetivo de ofrecer una atención multidisciplinar de aumentar la especialización la experiencia y la calidad del servicio que se presta cambios que nos sitúan en términos de atención a la altura de los estándares europeos en la atención oncológica pediátrica que

a nivel estatal específicamente en relación con el tema que estamos debatiendo a los estándares y recomendaciones para las unidades de oncología pediátrica asistenciales del cáncer en la infancia y en la adolescencia es más osakidetza ha participado en el grupo de trabajo

de salud en todo lo que esté orientado al objetivo de la mejora en la atención oncológica pediátrica

que se implantaron se han venido haciendo cambios y adecuaciones y nos consta que se va a seguir en esta línea continua dicho esto tampoco podemos obviar que también es necesario velar por mantener el equilibrio entre la accesibilidad la sostenibilidad la equidad y la sostenibilidad del sistema elementos clave a la hora de llevar a cabo la planificación sanitaria y de mantener nuestro sistema sanitario en unos adecuados índices y condiciones de calidad

un hospital es una organización muy compleja que debe dar respuesta a muchas pacientes muchos pacientes con patologías muy diversas y diferentes que cuenta con unidades y servicios múltiples y variados y que a pesar de lo complejo que es la limitación de recursos que también hay que decirlo bueno pues se intenta que tanto estos

respondan a las necesidades de las diferentes patologías y de los diferentes y las diferentes pacientes personas enfermas a fin que estén atendidas de la mejor manera posible

se van realizando mejoras y adaptaciones también en estas unidades de atención oncológica pediátrica y esta no es una mera afirmación que haga de cara a

me interesaba conocer las diferentes actuaciones que se han venido realizando y desde luego

muchas cosas se han llevado a cabo notables mejoras para ir avanzando en adecuar

unidades que no son suficientes seguro por eso es necesario seguir en esta línea de mejora continua yo no voy a entrar

con la más reciente por ejemplo en el hospital de donostia donde las cinco habitaciones individuales que forman la planta de hospitalización de esta unidad

rojo ya ha hecho referencia a algunas de estas adecuaciones y nos consta además como he dicho antes que están previstas

es poner en relieve la implicación del departamento de salud de osakidetza de los

unidades de referencia para ir adecuando las mismas a los nuevos retos y necesidades que van surgiendo tratando de optimizar los diferentes espacios disponibles

preocupación que hay por parte de los responsables sanitarios también en esta cuestión

a la complicada realidad para estos pacientes para sus familias una realidad que sin duda requiere de la mejor atención posible en las mejores condiciones

en esta dirección se van como digo haciendo cambios para adaptar los espacios para adecuar estas unidades a las necesidades que van surgiendo y previendo otras que pudieran surgir en función de las diferentes posibilidades de la misma manera que se ha actuado y se sigue actuando

lo he comentado al principio de mi intervención pero bueno disponemos ya de un nuevo marco de referencia el plan oncológico un instrumento que envía la actuación del departamento de salud de osakidetza en relación con la atención oncológica también con la atención oncológica

marco suficiente de actuación para impulsar las actuaciones que se quieren

y que van en la línea y dan respuestas a muchas de las preocupaciones manifestadas por las familias de estos pacientes

del grupo popular en el sentido de que se estudie la situación de las pacientes y los pacientes oncológicos pediátricos de álava que se desplazan

como ya se ha comentado estamos de acuerdo que se haga este estudio de hecho recogíamos también este aspecto en nuestra enmienda de totalidad

también lo ha dicho la señora garrido pero es así el departamento de salud los responsables de osakidetza están ya analizando esta

la valoración de las diferentes situaciones que tienen estas niñas

adoptarán en la medida que sea posible y viable las medidas oportunas por parte de los responsables sanitarios

se pueda facilitar una atención cercana por lo menos en cuanto a algunas pruebas al domicilio compartiendo por tanto la necesidad de que se siga avanzando por el camino por el que ya

y en adecuar en la medida de lo posible como digo la atención a los pacientes pediátricos alaveses hemos transaccionado hemos llegado a un acuerdo con el grupo popular que bueno ya han comentado

y que además no voy a repetir tampoco porque ya se ha hablado de él pero parece que va a ser apoyado

por unanimidad desde luego de lo cual nos alegramos sin duda

la importante labor que efectivamente realizan los padres madres las familias de estos niños niñas y adolescentes y enfermos oncológicos pediátricos a través de las diferentes asociaciones

incluidos y desde luego de las y los profesionales de nuestro sistema sanitario especialmente y específicamente quienes están día a día trabajando con ilusión y responsabilidad en estas unidades de oncología pediátrica

está orientado en el camino de la atención integral multidisciplinar coordinada y de calidad en la que

para avanzar en la mejora que siempre es necesaria para intentar asegurar a los pacientes oncológicos pediátricos también

bakartxo tejería andrea consejeros consejeras compañeros y compañeras muy breve es un buen acuerdo elkarrekin podemos apoya este acuerdo

que nos ha planteado la compañera laura garrido y es una alegría siempre que

en la defensa de la sanidad pública vasca dos breves comentarios y me siento la primera cuestión es que no estamos hablando de un problema de volúmenes importantes la tasa de mortalidad infantil que tenemos es de las más bajas del mundo

en el dos mil dieciocho hubo cincuenta y tres defunciones de menores de un año sin embargo como muy bien se ha explicado la importancia del cáncer infantil

familiar psicológica y de salud pública y mediática precisamente el enfoque de esta proposición no de ley es amortiguar en lo posible la transcendencia social del problema

sino la suficiencia de las infraestructuras que mejoren el confort y el impacto familiar el impacto social y psicológico del problema

es un excelente servicio desde que lo dirigió el difunto doctor rodríguez soriano en mil novecientos setenta y uno ha desarrollado

uno de los que da prestigio a osakidetza y a su buen hacer

la unidad onco hematológica infantil junto a otras catorce subespecialidades

y en mil novecientos noventa y tres se montó el hospital de día sabéis que las cosas fundamentales de la infantil leucemia

son tumores que se tratan de forma ambulatoria mayoritariamente por lo tanto el hospital de día es un elemento esencial además de las dieciséis camas que ahí se han ampliado que tiene cruces en este momento asignados a la unidad de oncología

la docencia la investigación y la capacidad asistencial

reconocimiento internacional estatal de excelencia y de calidad y sigue en la misma línea

inclusive hay un proyecto de pisos para alquilar para personas

otras zonas que necesiten que los niños y las niñas en tratamiento fundamentalmente como sabéis quimioterapia tengan más de un día de atención hay un excelente informe del cáncer infantil del servicio de vigilancia epidemiológica del departamento de salud que habla de la incidencia de la mortalidad y de la supervivencia del cáncer infantil en la comunidad autónoma vasca

cuatro cinco años y diez quince años de ciento cincuenta y seis coma seis casos por uno millón de habitante y cuando el denominador es

de enfermedades con un número limitado de casos

en el estudio del servicio de vigilancia epidemiológica entre mil novecientos noventa y dos y el dos mil doce

doscientos once casos en menos de un año murieron doce niños y niñas los

es la evolución de la mortalidad y

que es el criterio de calidad fundamental que utilizamos en los procesos de atención al cáncer en nuestros hospitales la mortalidad

ha disminuido en este periodo noventa y dos dos mil doce que es el último dato que tenemos

y la supervivencia de cáncer infantil sobre todo por la mejora en los tratamientos de la leucemia

en un siete por ciento después de cinco años del diagnóstico son buenos datos hay buena trayectoria vamos en buen camino

de atención al cáncer infantil puede ir mejor así pues la atención al cáncer infantil y con esto acabo

y así lo asume no solamente con los estudios epidemiológicos y el plan oncológico

sino porque asume su financiación su planificación su gestión y la garantía de la buena práctica clínica

que siempre respetamos y siempre hay que escuchar

y los mediáticos maratones de televisión radio etcétera a favor del cáncer infantil siempre bienvenidos como elementos de solidaridad social no es responsabilidad de las donaciones privadas asunto que debatiremos y contrastaremos la semana que viene

a favor del cáncer infantil que hemos conocido esta mañana entrañable hombre

que mueve conciencias pero no es su responsabilidad el tratamiento la calidad y la excelencia del proceso de atención al cáncer infantil

solamente acabar diciendo que es un buen acuerdo necesitamos saber de quién es cada responsabilidad necesitamos saber a quién hay que escuchar a quién hay que respetar pero quién debe gestionar el proceso

drama social bien en el cáncer infantil bien en otras enfermedades raras hay que estar muy atentos

sin embargo gracias el desarrollo del servicio de pediatría entre otros

pero también en algunos temas de tratamiento específico de cáncer

una alegría lograr un consenso de este parlamento que apoye que dé ímpetu a la capacidad de nuestro sistema público de prestigiar sus instituciones y de adecuar los recursos su financiación infraestructuras aun cuando la trascendencia social familiar y psicológica de los problemas

izango dela es una idea que repetimos constantemente porque estamos convencidas además de que realmente es así pero eso no quiere decir que no haya cuestiones que mejorar sobre todo en lo que se refiere a la oncología infantil a la

para ser más concretas mejoras urgentes que hay que acometer tanto en lo referido a los recursos humanos

en cuanto a la atención integral a las infraestructuras

a nivel territorial y décimos atención integral y eso sí que es importante atención integral significa según entendemos nosotros en todas las etapas en todos los momentos en todos los grupos en todas las personas en todos los agentes

desde el diagnóstico desde la entrada de ese niño esa niña a una vida que va a tener que vivir durante un tiempo

en el momento cómo no de la atención y eso no lo ponemos en duda porque sabemos como hemos dicho que están bien atendidos

desgraciadamente los niños las niñas fallezcan y ahí también hay que hacer una atención integral

y profesionales o en el caso incluso de que se recuperen

después de hacer salido de su entorno de su zona de confort del ámbito educativo eso también

integral esas carencias han quedado más que evidenciadas en las diferentes comparecencias que hemos podido escuchar a los diferentes portavoces

de debatir esta proposición no de ley porque podríamos haber visto de primera mano qué es todo lo que nos han trasladado y hoy estamos intentando contar han adelantado tanto la señora rojo como la señora otalora bueno pues parece que se han acometido ciertas mejoras ciertas

las reformas pero insisto esto estaba solicitado ya desde el año dos mil dieciséis

tanto para el departamento como para el gobierno es una gran oportunidad para avanzar en todo lo relativo a la prevención y a la atención

de esta cámara pero los planes también tienen que ser efectivos tienen que ser concretos tienen que ser realizables se tienen que desarrollar y además

económica y en este caso bueno pues no podrán negarnos que aunque esté recogido

que tomar la iniciativa para impulsar ciertas mejoras relativas al cáncer pediátrico y como también he dicho en otras ocasiones esto también es plan oncológico

eta sentsibleak daudelako no vamos a volver a repetir todo nuestro apoyo al reconocimiento a profesionales del tercer sector

sabiendo muy bien qué tienen que hacer y en cada momento porque también lo hemos hecho en muchas ocasiones también lo hemos hecho en la comisión ahora lo único que queremos hacer es apelar al gobierno pues para que cumpla cuanto antes lo que los grupos parlamentarios

que prioricen la mejora de las dos unidades de oncología pediátrica que solucionen los problemas

para facilitar la atención de estos niños niñas y adolescentes les pedimos que cuiden a sus familias para que estas puedan atender en condiciones a estos niños y niñas

lapurtu dute euskaltel enpresa lapurtu digute vengo a denunciar un robo

el robo de la empresa euskaltel porque nos han robado la empresa euskaltel a todos y a todas una empresa creada en el año mil novecientos noventa y cinco público con impulso político y con objetivos más allá de los meramente empresariales de carácter político y social en un sector

y llamada como decía a desarrollar no solo una actividad mercantil sino también para generar un plus

esa empresa generada con dinero impulso y objetivos públicos en mil novecientos noventa y cinco es hoy pasto de los buitres pasto de los tiburones más voraces de los mercados

ha pasado de ser una empresa pública en concepción y en propiedad a ser una empresa privada y objeto de las peores prácticas del capitalismo de casino

a una estrategia perfectamente planificada a una secuencia de acontecimientos diseñada para que se produzca lo que ayer se produjo o al menos ayer tuvo

del consejo de administración de euskaltel por parte de la empresa o del fondo

era una secuencia de acontecimientos tan coherente que era absolutamente predecible

en este momento hay que denunciar las diferentes responsabilidades de que este proceso se haya producido por acción o por omisión y a mi entender y al entender de nuestro grupo parlamentario los principales responsables de que hoy euskaltel

a ser una empresa privada en manos de especuladores son el anterior lehendakari

ellos con diferentes grados de responsabilidad pero por acción o por omisión son responsables de la situación en la que nos encontramos

de estos cuatro protagonistas podemos estar hablando en algunos casos de incompetencia o si no en otros de impotencia o quizás de indiferencia

de que se nos ha privado de una compañía pública en propiedad y en objetivos para como decía poner en manos de especuladores hace unos años teníamos euskaltel ahora tenemos euskaltel group y probablemente dentro de unos meses tengamos virgin spain en el tránsito de una situación se ha producido esa privatización se ha producido el enriquecimiento indecente de la dirección de euskaltel se ha producido un grave perjuicio en la calidad de vida y en las relaciones laborales de la plantilla de euskaltel y por supuesto también efectos perniciosos en toda la cadena de subcontratación

era no solo predecible sino que ya estaba predicho con pelos y señales porque era tan obvio lo que iba a pasar mientras que algunos miraban a otro lado y aplaudían que

no era difícil saber a qué nos abocaba el proceso en el que arrancó en el dos mil doce con la privatización de la red de fibra óptica

en dos mil doce el grupo de eusko alkartasuna al igual que hizo el grupo de aralar se opuso a esta privatización de la fibra óptica y a la venta de las acciones del gobierno y decía

a este respecto es importante señalar el hecho de que también kutxabank principal accionista de la empresa pretende deshacerse de un gran paquete accionarial lo que unido a los planes del ejecutivo

y en consecuencia el centro de decisión de la empresa salga de euskal herria con lo que las decisiones estratégicas de la compañía responderían a intereses ajenos a los de este país que perdería así una firma comprometida con su bienestar y su desarrollo económico esto se decía en dos mil doce

y mientras tanto qué es lo que hacía el gobierno de entonces y el posterior pues aplaudir colaborar vender acciones privatizar la red de fibra óptica y aplaudir también

ya ha pasado esto que se denunciaba la pérdida de arraigo porque euskaltel ya no es una empresa cuyo centro de decisión este en el país vasco las decisiones sobre euskaltel no se toman ya aquí no señora tapia no se toman ya aquí el lunes que viene hay junta de accionistas de zegona

porque usted se cree que los inversores de zegona van a pedirle al señor

que euskaltel invierta en patrocinios de fiestas populares que garantice la atención en euskera que esté comprometida con el país que haga las inversiones

una única cosa que de valor a su inversión y sí no da valor a su inversión en los términos que ellos le van a imponer le van a cortar la cabeza

que es el dueño de euskaltel es el que toma las decisiones de euskaltel y el que ayer nombro

para que no le corten a él la cabeza no va a reparar absolutamente en nada en nada con respecto a euskaltel porque el consejo de zegona se lo va a exigir a él y él se lo va a exigir al consejo de euskaltel y tenemos precedentes estamos en la segunda fase

y ya sabemos lo que es arreglar porque cuando salió a bolsa euskaltel en dos mil quince también se hizo un arreglo pero eso sí un arreglo de aficionados comparado con el arreglo

porque la empresa dentro de la empresa ya se tiene constancia de qué tipo de planes y qué tipo de informes se están haciendo y no se paran ante nada en estos momentos están realizando estudios no especulaciones hipótesis ni conversaciones en la máquina del café estudios

estudios sobre las fórmulas de reducción de personal y nuevos organigramas estudios sobre la venta de la sede hori guztia ez dakigu gauzatuko den ez dakigu gauzatuko den

bider ez dakit zenbat y quién metió el caballo de troya de zegona dentro de euskaltel porque zegona no ha aparecido del cielo

a zegona le ha metido alberto garcía erauzkin dentro de euskaltel

una decisión que no responde a ningún criterio económico objetivo una empresa que no había absolutamente ninguna necesidad de comprar y menos al precio desorbitado que se pagó en su momento una empresa que además llevaba dentro como en la peli de alien

porque cuando se va a comprar la empresa se hace un análisis de su rentabilidad no sé en base a qué se hace una tasación exageradamente alta y además se le da a zegona que era

de telecable el quince por ciento de euskaltel y ciento ochenta y seis millónes y

y te doy ciento ochenta y seis millónes qué espere que haga es como dejar a un mono en una habitación llena de plátanos

con el quince por ciento y liquidez qué te puedes esperar cuando es un fondo destinado a invertir en telecomunicaciones del estado español que solo tiene una inversión que es telecable y lo metes en tu casa qué te puedes esperar pues te puedes esperar lo que ha pasado ahora eta honen aurrean

es que es recochineo mientras estamos hablando de euskaltel es que

ha hecho algo kutxabank para intentar como este parlamento le ha solicitado que esas acciones queden en manos vascas le hemos invitado al señor villalabeitia y por eso hablo con dureza de él

sé que no tienen la obligación legal pero tenían la obligación moral de venir a dar explicaciones de lo que está pasando y de su responsabilidad

a justificar villalabeitia y erauzkin lo que están haciendo porque lo que están haciendo

a dar su versión yo desde aquí no me voy a ahorrar las críticas y este gobierno no ha tenido ni la voluntad ni la capacidad de intervenir con decisión en euskaltel no hay fondo no hay fondo de inversión todavía pero no hay fondo tampoco político en la

estamos viendo estos días cómo el estado francés ha intervenido con decisión en el proceso de fusión entre dos empresas privadas de una de las cuales

es accionista y como es accionista ha podido poner condiciones

porque a uno de los socios no le gustaban las condiciones que ponía el estado francés y esto sucede en la francia de macron con un gobierno liberal pero es que el gobierno vasco del pnv y del psoe es más liberal que el gobierno más liberal de europa porque el señor ministro de finanzas de francia dice francia ha defendido los intereses de los franceses y de quién ha defendido los intereses

de zegona diciendo que el arraigo no está en peligro haciendo de abogado del diablo

poniendo paños calientes en lugar de intervenir con decisión porque señora tapia comprar un pequeño paquete de acciones como se ha puesto encima de la mesa cuando la tormenta ya

queremos capacidad de bloquear este tipo de cosas porque en estos momentos en euskaltel no hay garantizada ni siquiera una minoría de bloqueo para el cambio de estatutos

que efectivamente hay determinadas cuestiones que se tienen que cambiar por vía estatutaria con una mayoría cualificada

en qué equipo juega tiene el veinte es verdad que está muy atomizado el veinticinco por ciento de la propiedad pero no sería difícil poner de acuerdo al cincuenta y tantos y si se hace una acción concertada incluso eso que es lo más blindado está en peligro pero le digo que eso tampoco es garantía ni de que las decisiones se tomen aquí que se tomen en londres ni de que las oficinas y la parte del empleo se vaya trasladado a madrid como el resto de telecos cuando se convierta

y nosotros también trajimos una propuesta de

luego antes de estar constituido se hace una operación con ese fondo o sea el cid ganó una batalla después de muerto ustedes utilizaron el fondo de inversión antes de constituirlo es algo parecido pero a la inversa antes de nacer ya estaba ganando batallas este fondo estaba comprando caf que todavía nadie ha explicado para qué queríamos un uno por ciento

luego llegamos a un acuerdo en este parlamento un acuerdo hoy he leído en la prensa enhorabuena señor damborenea espero que tenga más suerte

y anterior en el que me dieron un plazo para el fondo digo que espero que tenga más suerte porque yo quiero que se haga el fondo no quiero que el fondo no se haga para criticar al gobierno no

y no solo le pusimos un plazo sino también una serie de condicionantes que no sé si quedan derogados no sé si su acuerdo tiene cláusula derogatoria pero hace más de año y medio

que tiene párrafos como este un párrafo que yo llamo párrafo santillana del mar

pues este acuerdo prácticamente en cada frase hay algo que no se ha cumplido que no es cierto acordé con el gobierno vasco el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que presente en el parlamento no ha presentado

no está finalizada en el marco del primer semestre de dos mil dieciocho no se presentó y esto es lo mejor

hombre más transparente que el periódico no hay nada pero a través del periódico año y medio después de este acuerdo que me he enterado que hay una nueva fecha espero ya digo

compartimos buena parte del análisis y la descripción que ha hecho el señor casanova y también buena parte de la iniciativa que traen hoy a la cámara él ya lo sabe y también aunque

compartimos el tono más que justificado de cabreo que creo que hoy ha expuesto

el señor casanova hay una preocupación

de la empresa euskaltel es una preocupación fundada fundada por el control que de esta ha tomado el fondo de inversiones británico zegona

está bien fundada en nuestra opinión porque ya sabemos cuál es la operativa de este tipo de fondos cuando se hacen con el control de una empresa siempre con consecuencias negativas

de una empresa estratégica por el lugar que ocupa en el sector tan importante hoy de las telecomunicaciones en nuestro país este fondo de inversión dice que se dedica a comprar arreglar y vender y esto mentira lo que va a hacer este fondo de inversión en euskaltel es más bien comprar estrujar y largarse llevándose por lo tanto todo lo que pueda sacar de estrujar a euskaltel es decir importantes beneficios a costa de despidos externalizaciones endeudamiento de la empresa e incluso venta de infraestructuras y propiedades

los trabajadores de euskaltel es cierto ayer estuvieron en la comisión y están más que preocupados porque saben que esto es lo que se les viene encima con total probabilidad

prácticas de otros inversores privados de menor tamaño que han pasado por la empresa en estos últimos años ayer nos los describían con todo lujo de detalles

cree que quienes sostenemos este análisis de lo que está pasando y va a pasar en euskaltel somos imprudentes seguramente como en tantas ocasiones apelara a la necesaria confianza dando a entender que algunos somos desconfiados per se pero en nuestra opinión esto no es una cuestión

ni de desconfianza no es una cuestión de prudencia o de imprudencia se trata de analizar lo que ya está pasando y poder prever lo que va a pasar para actuar

pedir confianza y paciencia es en este caso una excusa para justificar que se está mirando para otro lado que el gobierno está mirando para otro lado

porque el gobierno no se siente capaz de hacer nada o tal vez porque el gobierno no quiere hacer nada en mi opinión y en opinión de nuestro grupo

una empresa rentable y creada con dinero público

del mercado hace ya unos años que la empresa euskaltel cuya creación pagamos a escote entre todas y todos las vascas y vascos con dinero público no es ya propiedad aunque fuera de manera indirecta de todas y de todos

que propietarios particulares mayoritariamente inversores capitalistas son los propietarios mayoritarios en esta empresa algo que desde nuestra coalición

ha sido debatido en este parlamento y en estos momentos la empresa euskaltel cuya creación como digo pagamos a escote entre todas y todos con dinero público no solo está en manos privadas sino que está ya en las peores manos privadas posibles y con un futuro incierto por no decir

nefasto al menos para los intereses de los trabajadores de euskaltel para los intereses de los trabajadores indirectos para las empresas que trabajan con ellos y también para los clientes de esta empresa supuestamente emblemática para euskadi y nefasto desde luego para el interés general de nuestro país nefasto para el interés general porque estamos viendo como el dinero público acaba sirviendo exclusivamente para intereses privados de unos pocos

inmoral de algunos tal y como viene pasando en euskaltel

desde que comenzó toda la política privatizadora de esta empresa lo que ahora está pasando con este fondo de inversión es un capitulo decisivo de toda esta trayectoria de privatización de recursos públicos de la que gobiernos y algunos partidos han sido son y creo que van a seguir siendo

va a seguir siendo desgraciadamente con el actual gobierno euskaltel hoy no existiría si no fuera gracias a dinero público dinero de nuestros impuestos

de las trabajadoras y los trabajadores que son los que más pagan al final por eso en opinión de nuestra coalición

un control y participación contundente desde lo público por su carácter estratégico en las telecomunicaciones y

y lo cierto es que la realidad actual de euskaltel es el resultado de una política concreta una política claramente neoliberal donde la administración pública actúa al servicio de intereses privados bajo la falsa argumentación de las bondades del llamado

el señor grajales portavoz del partido nacionalista vasco

donde el sector privado no puede y después deja en manos del sector privado el desarrollo de las empresas el gobierno vasco dedica recursos públicos en nuestra opinión en empresas y luego se desentiende de la realidad de esas empresas lo hemos visto en otras empresas como cel como sei o como otras tantas que también han pasado por esta cámara

utilizar el dinero público para generar una empresa estratégica en el sector de las comunicaciones para que el país disponga

es una buena decisión política al servicio del interés general crear una empresa estratégica con dinero público

hagan negocios con esos servicios ya no es una buena decisión política al servicio del interés general sino tal vez una buena decisión política

una mala decisión política y esto segundo es lo que hemos evidenciado que ha pasado con euskaltel no da tiempo a describir el histórico de lo que ha pasado pero yo les recomiendo a parlamentarias y parlamentarios que visualicen la comparecencia que ayer tuvo el representante

porque con datos hizo una exposición absolutamente relevante de cuál ha sido la trayectoria de euskaltel en los últimos años

de quién tiene la propiedad y el control sobre esta empresa estratégica creada con dinero público por eso para nosotros es importante hablar

hoy en nuestra iniciativa de buscar el control social

etcétera y por eso planteamos la necesidad de herramientas financieras públicas capaces de garantizar inversiones en las empresas estratégicas como lo es euskaltel para garantizar no solo el arraigo sino para decidir sobre el modelo de empresa y sobre los objetivos para que los objetivos sean

y si nos parece importante hablar de intervención pública en empresas estratégicas nos parece fundamental cuando hablamos de empresas como euskaltel repito que además de estratégica es una empresa creada con impulso público es decir por una decisión de las instituciones públicas

público por eso a nuestro grupo nos parece y seguiremos insistiendo que las políticas públicas a este respecto han de garantizar control social sobre este tipo de empresas y que para ello la banca pública es una herramienta

potenciar ayer nos decían también en la comparecencia los representantes de los trabajadores que si detrás de algunos problemas financieros de las empresas

los directivos de esas empresas no se verían abocados a determinadas operaciones es fundamental que exista un polo de banca pública con la que poder proteger a la ciudadanía y a nuestros ahorros reducir el imponente poder de la oligarquía financiera que actúa sobre este tipo de empresas y establecer líneas de créditos a sectores productivos relevante e intervenir en los sectores estratégicos en favor del interés general

para evitar que empresas creadas con dinero público como esta acaben siendo simplemente el negocio de los más rapiñeros del sistema que eso es
lo que está pasando en estos momentos en euskaltel eskerrik asko

en los tres años que llevamos de legislatura con esta empresa o con otras lo hemos reproducido unas cuantas veces y yo

el gobierno sí cumpla en el tercer trimestre del año que viene la creación del fondo de inversión público privada que nos anunció la señora consejera el día que tomó posesión al día siguiente en el cargo y nos explicó las líneas estratégicas del departamento y nos habló de la creación de este fondo

pero bueno yo espero que esta vez el gobierno sí lo cumpla

otro debate que es un poco que se está soslayando porque el señor casanova decía quieren que suba el valor de la acción

me da igual en qué empresa alguien compra acciones

que yo estoy abierto a todas las posibilidades pero sí me gustaría que se me pusiera ejemplos de funcionamiento

en esta fórmula y en esta materia claro el señor hernández es que luego nos dice también

a lo mejor todos estamos de acuerdo en que hay que crear un fondo pero no estamos de acuerdo en lo que tiene que hacer ese fondo yo no estoy de acuerdo en crear un ini vasco

eso que hacía franco eh el ini vasco con empresas no rentables

a costa de los impuestos de todos los demás al final para perjudicar a todos esa no era la idea con la que nosotros partíamos a la hora de crear ese fondo

clase de fondo estaríamos creando y luego viene el modelo de empresa porque yo estoy oyendo aquí algunos discursos

a medio largo plazo o kutxabank que lo mismo me da

puede sobrevivir compitiendo con todas las empresas del mundo mundial solo en el país vasco sí

yo creo que no que cada día vas perdiendo cuota de mercado y vas perdiendo cuota de mercado y vas perdiendo cuota de mercado pues si queremos tener empresas vascas que funcionen que

en las empresas no solo los fondos buitres esos que usted dice

y para eso tienes que competir abrirte y tener negocios pues euskaltel en toda españa también es que si no

a ver yo como concepto nacionalista pues bueno pues si quiere usted coge y lo plantea y cierra las fronteras se declara independiente y aquí solo opera euskaltel

importa que se pierda dinero porque como la banca es pública y no se sabe donde sale el dinero

por eso le digo a ver si estamos hablando de fondos de inversión distintos porque lo nuestro no es el ini el ini vasco

en fin el centro de decisión pues sigue estando aquí y

ahora si la mayoría de los accionistas deciden que es mejor para la empresa para darle valor a la empresa ha dicho usted para que valgan más las acciones

es que claro están para eso no están para que pierda valor no está para que se cierre la empresa

este es un debate que llevamos repitiendo que parece que todos décimos lo mismo cuando utilizamos determinadas frases

me parece que no estamos hablando de lo mismo y por lo tanto pues bueno yo lo que sí espero es que ese fondo se cree de una vez

sea rentable para estar en empresas rentables facilitar el arraigo de esas empresas aquí pero evidentemente esas empresas tienen que crecer y competir fuera

como los de fuera compiten aquí porque si no mal nos va a ir con todas las empresas

sí gracias presidenta egun on miren de las propuestas resolutivas de la iniciativa que ha presentado euskal herria bildu de cinco puntos

ustedes plantean en positivo la inversión para la compra de acciones de euskaltel y otra más genérica para el desarrollo de una política de inversiones significativa y sostenible

por lo tanto entiendo de su iniciativa que considera grave el asunto de euskaltel sobre todo fundamentándose en el arraigo pero tan solo dos

esas medidas urgentes y necesarias para el tema de euskaltel

hacía una serie de consideraciones específicas respecto al arraigo de euskaltel y comenzaba señalando que la salida a bolsa de la compañía se aprovechó para modificar los estatutos de euskaltel con el fin de garantizar una serie de elementos fundamentales para el arraigo definiendo qué era arraigo cómo hacerlo y exigiendo además un porcentaje excepcionalmente alto que no ocurre con asiduidad para precisamente mantener ese arraigo

y forman parte del arraigo el domicilio social el objeto social el cambio de la posible marca de euskaltel

la efectiva administración y dirección de la sociedad en euskadi que comprende además la sede social

el mantenimiento de los recursos personales el mantenimiento de los centros de trabajos el mantenimiento de los medios materiales y en definitiva el desarrollo de la actividad del operador de telecomunicaciones en euskadi y la propiedad de la red de telecomunicaciones

de estos elementos que les he comentado y la actual participación de kutxabank es del diecinueveochenta y ocho por ciento y teniendo en cuenta

de ese veinticinco por ciento que permite vetar cualquier cambio en los elementos del arraigo que tanto nos ocupan y tanto nos preocupan hoy el fondo de inversiones ostenta la mayoría con un veinte por ciento y la consejera hizo una declaración respecto al futuro de euskaltel como actividad industrial y señaló si en algún momento de la transición

vemos en riesgo la posibilidad de ese veinticinco por ciento del capital que no esté en manos adecuadas el gobierno tiene los instrumentos necesarios para poder actuar e intervenir

del partido nacionalista vasco y de los socialistas vascos y que hemos transado también con el grupo populares vascos

todos los recursos a su alcance para que esta empresa para que euskaltel tenga el máximo nivel de arraigo en el territorio vasco en aras a garantizar el compromiso con el empleo con la inversión con la investigación con el avance tecnológico y el desarrollo

también hemos planteado reiterar el compromiso aprobado en el pleno el pasado veintiuno de febrero hace algo más de tres meses

en la comunidad autónoma vasca la sede y la capacidad de decisión de euskaltel y otras empresas estratégicas y por eso instamos al gobierno vasco a kutxabank y a las fundaciones bancarias teniendo como objetivo un modelo productivo sólido saludable y sostenible en el país vasco que es también algo que reclamaban ayer

proponíamos desarrollar una política de inversiones significativa y sostenible en las empresas estratégicas

en euskadi y respecto a la estrategia para incentivar la localización de empresas vascas y también empresas extranjeras aquí en euskadi como una apuesta por el futuro industrial y empresarial en nuestro territorio instamos a mantener y mejorar las capacidades competitivas de euskadi para lograr optimizar su atractivo como territorio óptimo para el asentamiento y arraigo de empresas tractoras

mire los socialistas vascos en agosto del dos mil doce junto con el grupo nacionalistas vascos y el partido popular rechazamos en la comisión de hacienda las propuestas de

y también para la venta de las acciones de euskaltel propiedad de la administración entonces de la comunidad autónoma de euskadi el gobierno vasco en dos mil doce tras la autorización del parlamento vasco al gobierno para proceder a esa venta

hacer uso de la posibilidad de mantener una participación minoritaria inferior al cinco por ciento para velar por el mantenimiento de esa marca de la sede y del centro de decisión porque los socios que permanecían en euskaltel kutxabank e iberdrola

lo que suponía asegurarse que se velaba por el mantenimiento de las condiciones impuestas al inversor y lo digo porque parece que aquí se tomaron decisiones en esta cámara que venían sin mucho fundamento y no es así

bien y además ratificadas por este parlamento y desde aquel agosto de dos mil doce han sido varias las ocasiones en las que hemos tenido ocasión de debatir sobre

sobre las garantías de esa vinculación sobre el proceso de la salida a bolsa de su capital sobre la planificación para el fomento de la inversión pública

y sobre las medidas a adoptar para afincar en euskadi la sede y la capacidad de decisión de euskaltel y de otras empresas estratégicas

algunos acuerdos a los que hemos llegado por mayoría en esta cámara desde aquel agosto de dos mil doce porque son acuerdos legítimos democráticos

se ha estado trabajando en esa senda después de aquel rechazo a las propuestas de eusko alkartasuna y de aralar que querían impedir esa transmisión de la red de tele comunicaciones y la infraestructura de euskaltel miren en de dos mil catorce se aprobaba una enmienda en esta cámara transaccional presentada por socialistas vascos y nacionalistas vascos que instaba al gobierno vasco a trabajar e impulsar medidas que eviten la deslocalización de empresas radicadas en euskadi

manteniendo su vinculación territorial continúen actuando como empresa tractora del resto del sector de forma que además de mantener el empleo actual siga generando un nuevo empleo de calidad

así entre las empresas y la representación de los trabajadores respecto a la externalización de algún servicio caso de euskaltel se oriente hacia fórmulas que permitan mantener los puestos de trabajos y las condiciones laborales el ocho de octubre de dos mil quince

en la que el parlamento vasco se ratifica en que resultaron oportunas las autorizaciones concedidas al gobierno vasco aquel trece de agosto de dos mil doce para la transmisión a euskaltel sociedad anónima de la red de comunicaciones e infraestructura propiedad de la comunidad autónoma vasca

en tanto que suponía un reforzamiento como operador líder en el sector de telecomunicaciones que se facilitaría además su acceso a más fuentes de financiación y su crecimiento y desarrollo futuros el parlamento también aprobó que se consideraba que las prácticas de gestión empresariales debían de ser coherentes con la búsqueda de la mejora de la competitividad de las empresas pero también con la construcción de un modelo de sociedad

el parlamento vasco aprobó también que consideraba que la empresa euskaltel y sus equipos directivos tienen un compromiso con la sociedad vasca por el apoyo concedido por esta al nacimiento y desarrollo

que en sus decisiones estratégicas se mantenga la vinculación de la compañía con euskadi y se traduzca en creación de empleo y apuesta por el desarrollo de la innovación además el parlamento vasco aprobó que consideraba que la empresa euskaltel

se instaba al gobierno vasco a continuar impulsando la creación de nuevas empresas especialmente en sectores estratégicos y emergentes con la participación y asunción de riesgo empresarial

más cercano a las fechas veintidós de febrero de dos mil dieciocho aprobamos una enmienda por mayoría a la moción sobre planificación para el fomento de la inversión pública en empresas del sector que mostraba la preocupación del parlamento vasco de este parlamento vasco ante el proceso de venta de participaciones empresariales que estaba realizando la entidad bancaria kutxabank y se instaba al banco y a las fundaciones de las cajas a que no lleven este proceso de desinversión más allá de los límites preceptivos que marca la normativa europea

se instaba al gobierno vasco a que presentase en el parlamento la propuesta de inversión público privada que como se ha dicho

hemos asumido la enmienda que planteaba el partido popular respecto a esa creación de ese fondo público privado en el tercer trimestre de este año dos mil diecinueve y además se decía que el parlamento vasco instaba al gobierno vasco a hacer uso de los derechos que le dan los porcentajes de capital que tiene en empresas

para hacer un seguimiento de la actividad de la empresa y garantizar que esta actividad se desarrolle de forma adecuada desde la perspectiva de los intereses generales

la enmienda que transábamos con euskal herria bildu y elkarrekin podemos de esa enmienda que ustedes presentaban conjuntamente se aprobaba

y que correspondía íntegramente con uno de esos puntos que hoy también traemos en nuestra enmienda transada en la que se instaba al gobierno vasco a kutxabank y a las fundaciones

significativas y sostenibles en las empresas que sean estratégicas por tanto

todo un recorrido hasta el día de hoy desde el año dos mil doce durante varias legislaturas con diferentes gobiernos en el que los grupos parlamentarios por mayoría democrática por mayoría legítima nos hemos pronunciado hemos debatido y además hemos asumido junto con el gobierno una serie

de euskaltel que consideramos prioritario de las empresas tractoras que están en euskadi también

de euskaltel y por la disponibilidad de tener unas herramientas financieras eficaces y adecuadas para poder participar en esas empresas y velar también así por su arraigo

parte hartzeko de entrada está muy bien es una mutación interesante que nos permite darles la bienvenida de quienes defendemos las industrias y las empresas como bien imprescindible para generar empleo riqueza y en definitiva bienestar porque claro

para poder profundizar en la realidad empresarial vasca y ahora mismo están en la defensa ultranza no solo de las mismas sino en la defensa de que no se vayan

lo dicho bienvenidos al club ahora bien totalmente en el club pues todavía no les veo

ustedes se plantean el arraigo de las empresas a euskadi como una especie de concepción pastoril

y en las que ese arraigo va siempre acompañado de un incondicional amor

pero no en este mundo global quiero que se caigan del pino

que quiera tener continuidad no le queda otra solución que crecer

crecer para ser competitiva para que los que aquí vivimos arraigados contratemos con ella no solo porque es de aquí que eso también puede ocurrir sino porque nos ofrece precios y servicios competitivos el arraigo de una empresa

a esa arraigada empresa y menos cuando la competencia es elevada

que nos propongan al igual que la soberanía alimentaria esa de que los tomates de aquí

y no dejamos que entren los de allí una especie de soberanía telefónica soberanía

por eso para poder ser competitivos y mantener una empresa arraigada sí pero mantenerla que es lo primero hay que crecer y siempre puede llegar

única manera de lograr los fondos necesarios para ese crecimiento porque no hay empresa ni administración pública que pueda sostener inversiones del calibre de las que necesitan algunas empresas para competir enpresa kapitala handitu behar du bere lehiakortasuna areagotzeko

pues entre otras cosas el arraigo es y ha sido un elemento determinante en su actividad del inicio de sus operaciones ese arraigo

desde el punto de vista societario fue una empresa hecha por entidades vascas sí para que diera servicios a las gentes de euskadi

que había que dar más que esos servicios si se quería una empresa viable

una empresa vasca que daba empleo y servicio a los vascos debía crecer en un mundo amplio global y competitivo desde el noventa y cinco hasta diciembre del dos mil doce

ya se ha dicho aquí luego tenían el control de las decisiones estratégicas desde diciembre de dos mil doce con la entrada de los primeros fondos hasta julio del dos mil quince

con un derecho de veto recogido en un pacto de socios en las decisiones estratégicas con la salida a bolsa en julio del dos mil quince se aprobó previamente a la misma

definiendo además los mismos y exigiendo un porcentaje excepcionalmente alto para aprobar los acuerdos que pretendan modificar esos elementos

domicilio social objeto social cambio de marca para euskadi efectiva administración y dirección de la sociedad y la propiedad de la red de telecomunicaciones de euskadi

mínima para cambiar cualquiera de esos elementos de arraigo es un porcentaje del setenta y cinco por ciento luego un veinticinco por ciento puesto de acuerdo

aun habiendo reducido su participación kutxabank en el capital hasta el diecinueve coma ochenta y ocho por ciento diferentes fondos de gestión gestionados por la propia kutxabank fondos vascos de pensiones y accionistas vascos suman prácticamente ese veinticinco por ciento necesario incluso algunos accionistas que suman el quince por ciento

que no votarán en contra de kutxabank laburtzeko badaude enpresak bultzada publiko sortu ostean denean

aberastuz al tiempo y nos lo dijo la consejera arantxa tapia hace días ella ya se ha entrevistado con los nuevos accionistas con zegona y los mismos le han garantizado no tocar lo que

no obstante en nuestra enmienda le solicitamos al gobierno sabemos que no es necesario pero

todo lo posible para mantener el arraigo de euskaltel y ese todo lo posible incluye

porque desde nuestro grupo también entendemos que el arraigo de euskaltel es importante al tiempo que entendemos que el gobierno está haciéndolo bien no hay que reprocharle nada

de que quien quiera hacerse con partes de la empresa debe saber que euskaltel es de aquí ahora bien a pesar de todo podrían producirse situaciones delicadas que fuercen tensiones que habrá que afrontar además del potencial

otro fondo o no sé qué propietario de euskaltel puede tener el deseo de desubicar euskaltel

básicamente porque en otros lugares encuentre condiciones mejores que las de aquí que hoy por hoy es muy difícil pero puede ocurrir por ello le pedimos al gobierno que mantenga y mejore las condiciones de competitividad de euskadi para seguir y si es necesario aumentar

sobre todo la especializada la de alta tecnología esa es la mejor manera de lograr el arraigo de las empresas incluso de desarraigar de otros lugares a otras empresas

más o menos en el capital de las empresas no se trata de tener empresas públicas rehenes aunque pierdan dinero porque no es el caso

se trata de mantenerse en condiciones competitivas y de mercado no obstante puede producirse diferentes situaciones de riesgo de deslocalización y nuestra propia enmienda y el compromiso del gobierno

pacto que en cualquier caso es más importante que tener el tres o el cinco por ciento de la empresa beraz

para ello es más necesario que entrar en el capital que no dudo que también es importante trabajar para que este país sea atractivo en competitividad

y con altas cuotas de bienestar social en eso estamos trabajando y eso será lo que haga crecer euskadi y lo que animará al arraigo lo demás
son sutilizas de la dialéctica y de nuevo bienvenidos a la defensa de la empresa muchas gracias eskerrik asko tellería jauna erantzuteko

no me vuelva a dar la bienvenida señor tellería usted mismo ha reconocido que llevamos tiempo presentando iniciativa y le agradezco que me lo reconozca en defensa de las empresas de este país la bienvenido se da una o dos veces sino ya empieza a parecer un poco repetitivo es como es el chiste aquel de digamelón el que cogía el teléfono y decía siempre digamelón hombre la primera vez hace gracia luego ya yo sé que usted es una persona moderna además

no sea un hombre desactualizado la bienvenida se da lo justo no

el crecimiento no es lo único importante la cuota de mercado es importante también y hay empresas que sobreviven con una buena cuota de mercado en un mercado pequeño más que con un crecimiento

damborenea me lo ha planteado pregunten en una empresa que se llamaba fagor

por los pelos porque se ha salvado por los pelos del dogma de crecer por crecer

estamos hablando del control de la empresa y de la misión y de la función usted me habla de soberanía alimentaria cuando euskal herria bildu introdujo el debate político el término de la soberanía alimentario allá por dos mil doce aunque no lo inventó evidentemente era un término anterior el

luego el señor basagoiti pasó a la empresa privada después de la gracieta para que luego digan que el pp no hace nunca nada que perjudique a la empresa privada pues ahí se pasó el señor basagoiti a la empresa privada

autarquía de wifi autarquía de empresas que no entre nadie que no hombre que no

no caricaturicen esto no va de autarquía de empresas ni de mercados cerrados esto va de proteger el arraigo de una empresa usted que es de bilbao como yo entenderá bueno yo soy de barakaldo pero será del athletic me imagino

maite zaitu herriak porque surgiste del pueblo te quiere el pueblo y porque euskaltel surgió de donde surgió tiene la cuota de mercado tiene el arraigo y es la empresa que es exactamente igual que las cajas

no por cuestión de tamaño no no porque la gente la percibe como cercana

y porque dan un plus que no es un plus del valor de la acción sino que es una empresa que se ve como útil a la sociedad

la vemos más cercana porque el dinero se queda en este país porque es de aquí

y arraigo es también a parte de lo intangible arraigo es por ejemplo lo que se hizo cuando se desarrolló la red de fibra óptica porque no estamos hablando de pájaros y flores estamos hablando que en fibra óptica

que puso en marcha esa empresa y ahora hay otras revoluciones técnicas en marcha

y los gobiernos serios se toman muy enserio la defensa de sus empresas y no hablan de autarquía le decía que el ministro de finanzas francés ha dicho francia ha defendido los intereses de francia

por supuesto que es lo que tenemos que hacer defender los intereses de este país sin autarquías entendiendo que empresas de aquí invertirán fuera y empresas de fuera invertirán aquí pero sin perder el arraigo

es que la presidenta de huawei está en la cárcel en canadá es que al presidente

lo metió en la cárcel en japón presuntamente por corrupto pero seguro seguro porque japón no estaban muy contentos con el trato que le estaba dando a nissan en la alianza

no es serio no es serio la retahíla de acuerdos que se han hecho aquí para aplaudir decisiones que una forma clara y manifiesta nos están conduciendo

esto en un país normal no pasa no pasa es que aquí estaría no solo un grupo o dos

es que este tipo de decisiones de malas decisiones que conducen a resultados como estos en empresas estratégicas tienen consecuencias

nosotros hemos venido aquí con propuestas constructivas y cuando hablaba de que tenemos diferentes concepciones de lo que pueden ser los fondos de inversión

espero que se cumpla otra parte cuando se dice que los fondos buscan el arraigo territorial y el acompañamiento en la gestión

garantice que compartan esos objetivos y en el sexto punto de ese acuerdo firmado también en la mayoría de esta cámara dice

se desarrolle de forma adecuada desde la perspectiva de los intereses generales y de la política industrial

no hubieran entrado estos porque usted me dice el inversor quiere valor de la acción no sí y no sí y no

revalorizando la acción a corto plazo u obteniendo dividendos obteniendo una inversión a más largo plazo porque no lo es lo mismo inversor que especulador

busca una permanencia y lógicamente busca ganar dinero el especulador lo busca hacer a corto plazo y a costa de lo que sea incluso de cargarse la empresa y esa es la diferencia que no han venido inversores a euskaltel han venido especuladores y el precio de su especulación lo vamos a pagar todos

como lo pagaron el anterior proceso de salida a bolsa y como lo vamos a pagar como sociedad cuando los instrumentos que deberían estar a la vanguardia

mejor que yo de la industria cuatro punto cero la interconectividad que todo se va a basar en las telecomunicaciones

perder instrumentos vitales para ser vanguardia en un campo estratégico y tractor del resto de la industria

de la empresa que tenía que liderar ese proceso pues mira

los portavoces de partido nacionalista vasco y de partido socialista nos hacen nos han hecho un breve recorrido

que se garantiza esa capacidad de veto a la pérdida de arraigo y a la toma de decisiones importantes que puedan perjudicarnos

se han tomado decisiones que han perjudicado al interés general pero que han perjudicado de manera muy directa a las trabajadoras y los trabajadores

con esos porcentajes que supuestamente son suficientes para garantizar evitar ese tipo de actuaciones y a mí no me daba tiempo en el anterior intervención a describirlas

la intervención de comisiones obreras en la comisión de desarrollo económico de ayer

bien explicadas operaciones en la empresa que han supuesto auténticos pelotazos

que también auténticos pelotazos que se han hecho a través de devaluar las condiciones de los trabajadores que se han hecho a costa de descapitalizar la empresa y que se han hecho a costa de generar una importante deuda en la empresa

y hay quien ha ganado mucho dinero con esto algunos de ellos inversores que eran más pequeños que el actual inversor buitre del que estamos hablando y que por lo tanto desde nuestro grupo tenemos claro lo que va a pasar con este inversor y no hay ninguna garantía en estos momentos

para mantener ese veinticinco por ciento que además no es tal que ustedes plantean porque ustedes dan por hecho que diferentes pequeños inversores van a estar siempre alineados con esas posiciones y no tienen ninguna garantía de esto

la cuestión de la propiedad no estamos hablando de nacionalizar una empresa porque sí

concepción exclusivamente ideológica estamos hablando de una empresa que era pública o que fue generada con dinero público y que la situación actual

que estamos señalando un camino nefasto para los intereses de los trabajadores y del interés general del país

en recuperar aquello que jamás debió perder el control sobre esta empresa que efectivamente es estratégica en el mundo en el que vivimos una estrategia de una importancia fundamental la de las comunicaciones

de que euskaltel no crezca o de que euskaltel no se pueda dimensionar pero hay diferentes formas de dimensionarse y sí claro

quieren ganar dinero pero nosotros pensamos que se puede tener propiedad en empresas con otros objetivos pero para eso tiene que ser un propietario o una parte de la propiedad pública porque desde lo público se pueden marcar objetivos de interés general es verdad que desde lo privado seguramente quien entre en una empresa tiene exclusivamente objetivos

pero desde lo público se puede actuar en una empresa en favor del interés general y eso no necesariamente quiere decir que la empresa esté abocada a unos malos resultados y la situación de euskaltel efectivamente no es mala y es una empresa que podría tener futuro nosotros lo que proponemos es eso exactamente que se actúe desde lo público para que euskaltel pueda cumplir esos requisitos

al interés general porque si no lo que va a pasar es lo que venimos diciendo que con dinero público que hemos puesto entre todos dinero público para que algunos pocos ganen mucho dinero a costa de todas y de todos las empresas no solo se sostienen porque crezcan tendiendo al

las empresas se pueden sostener con una buena gestión y en función de intereses que no sean solo los intereses de ganar dinero quien entra

su objetivo no es exclusivamente ganar dinero es ganar dinero a través de un método que es el de estrujar la vaca compro la vaca y me deshago de ella no van a tener a la vaca en un buen prado en buenas condiciones para dar buena leche la van a estrujar

y en ese camino se van a quedar sobre todo los trabajadores y el país va a perder la posibilidad de tener una empresa que pueda dar servicios de comunicaciones al interés general de la sociedad

basagoiti volvió al banco del que había venido él

su abuelo igual también trabajaba en ese banco pero él también trabajaba en ese banco dice que empresa del pueblo oiga vamos a ver pero esto no lo había creado el gobierno vasco no eran las instituciones o qué pasa o euskaltel salió

pues esto no fue así es más algunos sí sabemos cómo fue y no tuvo nada que ver con eso

claro cuando usted tiene me da igual que sea un banco o una compañía de teléfonos que tiene una cuota de mercado en su territorio del sesenta o del setenta por ciento por eso le cita a kutxabank

y empiezan a competir todas las multinacionales del mundo mundial y usted va perdiendo su cuota de mercado poco a poco en ese territorio

lo cual implica que sale se abre tendrá que buscar socios en esos sitios porque todo el mundo el arraigo en su pueblo lo tiene muy metido no se crea usted que los de castilla no lo tienen también muy metido o los de asturias o los de

tendrá que buscar socios claro eso es lo que pasa y eso pasa con las empresas grandes que había aquí incluido kutxabank

incluido kutxabank entra con la cuota de mercado del setenta por ciento va bajando subimos los sueldos

y hasta dónde hasta cuándo hasta cuándo por eso le

ampliemos la cuota de mercado si aquí ya no va a crecer más y lo que está haciendo es perder tendrá que salir fuera tendrá que salir fuera

el valor de la acción le da absolutamente igual ese no se beneficia del valor de la acción ustedes han dicho que estos quieren incrementar el valor de la acción y yo he dicho coño por supuesto es que no conozco a nadie

que quiera que el valor de la acción se reduzca hombre

invirtiendo para perder dinero en ningún sitio y por supuesto que el que invierte en una empresa

lo hace planteando que va a ganar sabe que corre el riesgo pero su interés y por el que entra es para ganar

salvo que en bildu tengan otra mentalidad distinta pero no les veo a ustedes invirtiendo como locos en ningún sitio que pierda dinero

como santo tomás que les veo a usted a todos ustedes invirtiendo en empresas que pierden dinero

y entonces bueno igual me lo creo igual me lo creo algo un poco

y tiene las garantías suficientes para en esta vida

pueden pasar muchas cosas y por muchas garantías que se pongan o se dejen de poner pues pueden ocurrir muchas cosas incluso no previstas ni por usted ni por mí pueden ocurrir

y en cualquier caso le diré que la consejera me ha dicho que sí que este verano crea el fondo eskerrik asko damborenea jauna

para finalizar este debate yo lo que sí pediría es sobre todo respeto a las decisiones democráticas que se van adoptando en esta cámara

nos reiteramos una y otra vez en los debates y parece ser que aquí no se ha tomado ninguna decisión y seguimos reiterando reiterando debates y parece que

de haber adoptado por mayoría una serie de acuerdos bueno pues es lo que tiene las reglas del juego democráticas que se adoptan decisiones y compromisos

yo creo que efectivamente nadie tiene la razón absoluta en cuanto a la eficacia de sus acciones ayer mismo nos lo dijeron los sindicatos cuando

duramente además el acuerdo que había promovido comisiones obreras con la empresa euskaltel para el tema de garantías laborales

externalizada y nos venían a decir que lo que en dos mil catorce fue una desgracia

bueno pues el tiempo va quitando y poniendo razones

ejercer una política de mantenimiento del arraigo de las empresas estratégicas y tractoras que operan en euskadi y en el mercado global y que creemos que además el gobierno vasco tiene que utilizar todos los recursos a su alcance para que euskaltel o bien otras empresas que sean estratégicas o tractoras

la localización idónea y óptima para ejercer y desarrollar esa actividad empresarial y fundamentalmente para mantener su arraigo

de una política de inversiones significativas para el arraigo de ese tipo de empresas se lo hemos solicitado nuevamente al gobierno vasco y también a kutxabank y aunque ya lo debatimos en su momento es verdad que se hace imprescindible

y esperamos y confiamos en que esa información privilegiada que tiene el señor damborenea de cuándo se va a crear el fondo

de este mismo año dos mil diecinueve tal y como lo hemos reflejado y recogido en la enmienda de transacción y ayer después de las comparecencias tanto del sindicato comisiones obreras como el sindicado

que valorasen desde su punto de vista la situación de euskaltel a mí sí me gustaría también poner en claro que compartimos con ellos

con el tema de euskaltel y con otras empresas se trata de generar valor de generar riqueza pero también para la parte social para el personal directo e indirecto y que

un retorno de ese valor a la sociedad generando además nuevas oportunidades para el tejido empresarial y también compartíamos con ellos que es verdad que el arraigo es muy importante pero que además es más que la mera cotización que además se trata de generar valor y que es importante además tener

tener un futuro empresarial viable y sostenible en el tiempo que es algo que

minuto sí que se comentó y por último los socialistas vascos estamos de acuerdo

en que no se debe ir a maximizar beneficios a costa de todo de todos o a costa de cualquier cosa pero sí concluían con una frase que yo la recogí y que además la comparto plenamente y es que intentar
el arraigo de euskaltel era lo prioritario y en eso está el gobierno y en eso está esta cámara con sus acuerdos nada más eskerrik asko corcuera

a falta de comer bebo un poco porque a estas horas mire señor casanova enseñarle a manejar spotify no es moderno es casi vintage

viejo y seguramente porque soy viejo

por dos razones porque se me ha olvidado la anterior y porque me he llevado tanta sorpresa por sus cambios

esta corbata fue moderna hace veinticinco años hoy es vieja mire

de hablar es de tener empresas no necesariamente públicas por cierto los robos se denuncian en la fiscalía

lo que le decía se trata de tener empresas y fíjense todos ustedes en las empresas que se han creado en euskadi las que se siguen creando en cómo crecen con cómo crean empleos fíjense en la política industrial que está provocando crecimientos de empleo en pib etcétera etcétera eso es lo que hay que fijarse no si en

fondillo que por cierto todos los fondos lo que quieren es ganar como dice el señor damborenea también itzarri

también querrá ganar no me imagino que no le dirá a sus trabajadores oiga vamos a meter este fondo que es muy chuchi para perder pasta eso no ocurre y fíjense en la empresas

además están comprando empresas en el extranjero esta misma semana

una empresa en suecia avs de elgoibar ha comprado a su competidor norteamericano y esto se acabó

de qué los parlamentos de esos países se hayan reunido para pedir al gobierno que defienda a las empresas que han comprado

porque en resumen no sé muy bien exactamente qué es lo quieren no sé muy bien qué hablan cuando hablan de arraigo de hecho ayer se lo preguntaron

hablan de una empresa que siga teniendo la capacidad de decisión en euskadi nosotros también

o hablan que es lo que creo que hablan de un control público de la empresa para que se le considere algo así como parte de las instituciones como otra empresa pública y que sus trabajadores

empleados públicos pues yo creo que en eso discrepamos porque estaríamos hablando de cosas muy diferentes y euskaltel no es una empresa pública no lo es ni debe serlo

hasta ahora lo ha hecho se debe a una intervención pública evidentemente que en algún momento había que ceder porque euskaltel

como lo dan decenas de operadores telefónicos en todo el mundo y el arraigo que debe tener no es más que el que he dicho de estar la sede aquí de tomar las decisiones aquí porque incluso se han fijado ustedes no no ha salido aquí pero ni el parlamento vasco representante de los ciudadanos

su telefonía ni el gobierno vasco el representante el órgano representante de los ciudadanos no ha contratado con la empresa que como ustedes han dicho se creó con el dinero de todos los ciudadanos pues mire

el mundo competitivo porque en el fondo el debate es el modelo de empresa ese es el debate ustedes creen que sino todas

o porque sí euskaltel y sí la naval y no no sé

por qué no porque unas sí no tienen el criterio definido nosotros

y en determinados momentos cuando haya una necesidad especifica estructural y haya fondos públicos impulsar determinada empresa para que se cree

que genere un nuevo modelo como se ha hecho con la gamesa

mire señor hernández nos ha pedido dos veces que escuchemos

y yo también le invito le invito a usted a que escuche cuando yo le leí las dos propuestas de resolución que hemos traído hoy de transacción y hombre me agradeció le dijo me dijo y usted es testigo que estaba muy bien no me felicitó

que si el representante de comisiones obreras que usted ha apelado a que hay que escucharlo detenidamente dijo que la propuesta de resolución que hoy traemos aquí está muy bien
lo lógico es que usted también la apoye muchas gracias eskerrik asko tellería jauna